cuestiones y es que claro además actuaciones como las de la semana pasada tampoco ayudan a que esta idea

un director miembro y exdirigente del pnv y me explico una empresa propiedad de un miembro del pnv que emplea a miembros y cargos del pnv contrata casi en exclusiva con administraciones del pnv la administración del pnv solicita un informe de legalidad aun miembro y exdirigente del pnv

que emplea a miembros o cargos del pnv hori da ese es el resumen pero claro si eso les parece a ustedes normal pues bueno

del pnv sí sí sí de cinco miembros tres son altos cargos del pnv y la copa sin embargo en el mayor órgano fiscalizador de este país se la lleva el tribunal vasco de cuentas públicas cuyo presidente

hizo en su día y ese es el problema que hay en este país eta hori da herri honetan dugun errealitatea

intervención usted va a hacer una mayor autocrítica y va responder a la pregunta planteada yo solo le digo que es necesario sacudir alfombras abrir ventanas para ventilar llevamos tiempo insistiendo en la necesidad de una regeneración democrática porque

al menos aspiramos a construir no tienen cabida este tipo de prácticas tenemos mucho que avanzar asko dugu gai honetan pausuak emateko eskerrik asko estarrona jauna

onartu eta aplikatu egin ditugu señor estarrona usted pretende retorcer la realidad mezcla unas cosas con otras utiliza medias verdades oculta información y está claro que su única pretensión es bloquear la acción y desgastar al gobierno

yo le puedo asegurar que este gobierno no va a perjudicar ni va a beneficiar a nadie en ninguna contratación pública tampoco en los procesos de selección de personal

fundamentalmente en la crítica permanente y el bloqueo de las iniciativas que el gobierno adopta también en este sentido en relación por ejemplo a la comisión ética al código ético señor estarrona es legítimo pero con pocas aportaciones en positivo a su yo veo que no hay ninguna aportación en positivo no hay una intención de mejora todo su propósito se guía últimamente por el cálculo de su rentabilidad político electoral a mí me parece que ustedes a juicio de la mayoría de la sociedad vasca no resultan creíbles

lo sabe señor estarrona es lo único que puedo decirle nosotros no vamos a perjudicar ni vamos a beneficiar a nadie actuaremos como siempre lo hemos hecho y en todos los casos que puedan ser
siendo los primeros en poner la información a disposición también de este parlamento como lo hemos hecho eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna en las últimas semanas el gobierno ha traído

además son muchas las leyes que están en este pleno en esta cámara en pleno trabajo cuántas de estas leyes espera usted aprobar teniendo en cuenta los tiempos de trámite parlamentario

es la segunda vez que le planteamos esta cuestión en una sesión de control porque si algo ha caracterizado esta legislatura es el bajo nivel de actividad legislativa

que no tenía confianza en que las leyes que no hubieran traído en ese momento fueran a salir pero en este momento ni siquiera parece que las que ya están en el parlamento y están trabajadas pudieran ser aprobadas

a nosotros nos parece un error tal y como he dicho cuando se me ha preguntado creemos que la legislatura

que euskadi merece que sean aprobadas entre ellas hay que destacar dos que tienen que ver

uno la ley de igualdad es urgente mejorar el marco legal para prevenir y luchar contra las violencias machistas así como poner las bases para avanzar en la igualdad real las mujeres de este país

y mejorar el balance legislativo porque creemos que eso es bueno para euskadi

aprobar las leyes señor martínez corresponde a esta cámara y en este momento hay veintinueve iniciativas en tramitación pendientes de aprobación en esta cámara

ha aprobado diecisiete anteproyectos de ley y se han tramitado cinco proposiciones de ley más

el próximo martes aprobaremos dos nuevos anteproyectos juventud y cuerpos y escalas de la administración serán remitidos al parlamento ahora bien admitamos que si no se manifiesta una actitud de mayor disposición por parte de los grupos las posibilidades de aprobación serán escasas algunas iniciativas están desde el año dos mil diecisiete todavía

no he ocultado nunca las dificultades de un gobierno en minoría señor martínez el ejemplo lo tenemos en este caso proyectos aprobados por el gobierno que llegan a esta cámara y no acaban de ser aprobados por la situación de minoría de los dos grupos que apoyan al gobierno

dilatorias de los grupos de la oposición en algunos casos en todo caso invoco el interés social de los proyectos aquí presentados para que mediante un trabajo comprometido y conjunto los grupos puedan consensuar la aprobación del mayor número de leyes posibles ahora

el gobierno va a seguir cumpliendo su compromiso aprobando anteproyectos de ley en el consejo que se remiten para su tramitación a esta cámara

una inversión positiva se trata de un trabajo adelantado que en el momento oportuno contribuirá en todo caso a seguir avanzando en la aprobación de leyes en este sentido señor martínez ni un solo día de la legislatura se puede considerar inhábil queda claro que si existe voluntad

con muchas oportunidades para seguir acordando y aprobando proyectos de ley y proposiciones de ley señor martínez en este parlamento eskerrik asko

presidenta señora consejera uno de los compromisos que se reflejan en el programa del gobierno de esta undécima legislatura concretamente el sexto

la participación de las personas trabajadoras en sus empresas con respecto a la participación e inclusión de los trabajadores y trabajadoras en las empresas

al desarrollo de un modelo inclusivo participativo de empresa hemos podido corroborar que en los presupuestos aprobados por el ejercicio dos mil veinte para el ejercicio dos mil veinte existe la partida correspondiente para responder a esta demanda

sobre qué ha hecho el gobierno vasco para promover el diálogo social y la concertación somos conscientes de las dificultades con las que nos hemos encontrado en nuestra comunidad autónoma a la hora de establecer cauces para el desarrollo del diálogo social

de parte de algunos agentes sociales sobre su alcance y contenidos eso y otros inconvenientes han sido felizmente superados en esta legislatura

de los agentes sociales sobre la protección del ámbito vasco de negociación colectiva que a su vez era fruto del acuerdo alcanzado en la reunión de la mesa del diálogo social

en aquella reunión se sentaron las bases de lo que sería la creación de un órgano permanente del diálogo social la fórmula elegida para la institucionalización de este órgano fue la aprobación del decreto tres barra dos mil diecinueve de quince de enero de creación de la mesa de diálogo social en la comunidad autónoma del país vasco posteriormente

una reunión ordinaria de la mesa de diálogo social en la que se establecieron unos objetivos generales y un plan de trabajo a desarrollar a lo largo del año dos mil diecinueve el órgano tripartito constituido por gobiernos sindicatos y organizaciones empresariales

en cinco grupos de trabajo que abarcan las siguientes materias igualdad de género coordinado por emakunde empleo coordinado por el departamento de empleo y políticas sociales

e industria dinamizada por el departamento desarrollo económico e infraestructuras

tanto la creación de este órgano permanente mediante decreto como la conformación de dichos grupos de trabajo esta misma semana se ha reunido el pleno de la mesa de diálogo social por lo que quiero aprovechar esta

nos dé cuenta de los acuerdos más relevantes alcanzados en los grupos de trabajo constituidos en la reunión del once de febrero del dos mil diecinueve y que han sido trasladados a la reunión

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi señora sánchez como bien ha dicho usted la aprobación en esta legislatura del decreto que daba luz a la creación de la mesa de diálogo social en la comunidad autónoma del país vasco

que nos acerca a las sociedades más modernas y avanzadas de la unión europea que se caracterizan por la institucionalización de los órganos tripartitos de concertación social además le puedo asegurar que se ha configurado como una herramienta absolutamente eficaz para desarrollar el plan de trabajo

de once de febrero de dos mil diecinueve debido a la premura de tiempo voy a tratar de sintetizar y resaltar aquellos aspectos más relevantes del trabajo realizado a lo largo del año dos mil diecinueve han sido veinticinco

y fruto del diálogo se han alcanzado importantes acuerdos consensos y valoraciones compartidas entre los tres estamentos representados en la mesa confebask comisiones obreras ugt y gobierno vasco hemos elaborado los documentos

les señalo al grupo de igualdad le corresponden tres encaminados a reducir la brecha salarial y se refieren a la relevancia estratégica y la concienciación en relación con la conciliación corresponsable la necesidad de superar los sesgos de género en las vocaciones y opciones profesionales y a facilitar la formación de comisiones de igualdad para la elaboración de planes de igualdad que sirvan de guía para su implantación en la negociación colectiva

en uno se refleja la posición común de los agentes sociales sobre la evaluación intermedia de la estrategia vasca de empleo

y en el otro se han acordado las bases comunes en relación a la elaboración de una futura ley del sistema vasco de empleo también ha habido acuerdo respecto a la formación profesional

aprobada por este parlamento y se han conseguido definir las prioridades para un mejor desarrollo de la misma el trabajo en el grupo de salud laboral se ha centrado en potenciar la cultura preventiva en la pequeña y mediana empresa para ello se ha acordado la creación de un observatorio que diseñe y desarrolle planes específicos para las pymes teniendo en cuenta su dispersión y la falta de delegados y delegadas de prevención en las mismas por último en el ámbito de la industria se considera fundamental afrontar el reto que supone para la industria vasca la transición y desarrollo de la industria cuatro punto cero

que fomente un marco de colaboración tripartito que desde el consenso permita una respuesta social y empresarial

en la mesa se han acordado los principios en los que debe basarse ese pacto social vasco estos han sido los acuerdos alcanzados en los grupos de trabajo y que han sido validados por la mesa de diálogo social esta misma semana mi evaluación de este año no puede ser más positiva y estoy segura de que el trabajo de la mejora de las condiciones de nuestro tejido productivo en todos los aspectos va a continuar en los próximos ejercicios de momento en la reunión del pasado martes aprobamos también el plan de trabajo para este año dos mil veinte de la mesa de diálogo social no me queda sino agradecer a todas las personas

respectivas instituciones y organizaciones han hecho posible con su esfuerzo este elenco de logros que es el resultado de la apuesta por la concertación

señorías señores consejeros consejeras yo le

no es agradable para usted y le aseguro que tampoco es nada agradable para mí tener que preguntarle

separar el perfil institucional que usted tiene y el de su partido y por tanto hacer una separación entre lo que es el pnv y lo que son

y le preguntamos sobre algo que ocurre y que es exactamente todo lo contrario y que da esta impresión

entre el partido y el gobierno o de una aparente utilización de las instituciones como si fueran órganos de su propio partido y esto es lo que parece suceder y son los hechos y usted ha visto que hay un grupo de empresas el grupo montai que es de aitor elorza que es conocido de ustedes porque es miembro de su partido y ha ocupado distintos cargos

que ha recibido en los últimos cinco años trescientos setenta y siete contratos

muchos de los contratos vienen del departamento que usted gestiona

cuando se superaba el límite para poder hacer concurso se fraccionaban los contratos esta empresa ha venido contratando también con otras instituciones gobernadas también por el mismo partido

apenas unos días antes de que se iniciara la exposición de gogora y que recibió sesenta y seis contratos

no tenía una empresa sin medios ni trabajadores se creó exactamente para eso para recibir esas adjudicaciones esto es lo que parece verdad lo que nos dicen

a nosotros nos preocupa ese grupo de empresas además es el grupo de empresas que contrata el pnv para la organización de esos actos y de sus eventos

pero parece que sí que hay una confusión y este es un asunto que preocupa y yo no le voy a achacar a usted nada

y solo contratan con las instituciones del pnv a la misma empresa que trabaja para el pnv cómo es posible eso alguien dio alguna instrucción

por qué los departamentos que están gestionados por el partido socialista no tienen ni una sola contratación alguien podría decir

usted no puede ser uno más usted no puede responder como cualquier otro usted no puede aguantar que alguien diga en la calle oiga urkullu era como todos y se lo digo yo

nosotros también teníamos una persona que nos organizaba los actos y que le contrataban también en instituciones porque organizaba otros actos

y ya no son los hechos sino cómo reacciona usted y si de verdad está dispuesto a no permitir que estas cosas sucedan porque suceden en su departamento eso es lo que yo quiero oír no la respuesta estarrona que lo que ha hecho es arremeter contra él oiga no arremeta contra él esto está ocurriendo

y no encargar un informe de parte a una persona de parte para taparlo todo y yo ahora le voy a ayudar y le voy a decir si usted le da tiempo a la legislatura

afrontar la situación con absoluta seriedad y con absoluto rigor solo contratan las instituciones del pnv hombre yo le pediría que tuviera un poco más de memoria de usted incluso como grupo parlamentario que apoyó a otro partido político diferente al del partido nacionalista vasco en una responsabilidad de gobierno y que también contrataba con esta misma empresa

la actuación del gobierno ha sido transparente y rigurosa y si todos los grupos parlamentarios como es lógico conocen los contratos es gracias al portal de transparencia impulsado por el propio

intervenir también mire fueran los propios órganos de

y el gobierno remitió a este parlamento a este parlamento hace una semana un informe que abordaba con precisión la normativa sobre contratación pública y en particular la regulación de los contratos menores no se trata de un informe complaciente de parte ya que detecta un margen de mejora en la realización de este tipo de contrataciones e incorpora una serie de recomendaciones el gobierno las tomará en consideración y las pondrá en práctica a través de las iniciativas oportunas ahora bien este informe deja claro que no

ningún tipo de ilegalidad en todo caso la normativa sobre contratos menores recogida en el artículo ciento dieciocho punto tres de la ley de contratos del estado

hasta el punto de que ayer ayer señor alonso ayer mismo entró en vigor el real decreto ley tres barra dos mil veinte de cuatro de febrero que reconoce

resulta urgente y necesario por razones de seguridad jurídica solucionar los graves problemas técnicos que el artículo ciento dieciocho punto tres plantea

la nueva interpretación de este artículo permite concluir que la actuación desarrollada por el gobierno vasco ha sido más estricta y garantista incluso que la que se derivada de la anterior interpretación

en determinados contratos pero es necesario recordar que el gobierno vasco ha realizado miles de contratos de esta naturaleza en estos últimos siete años que me cabe la responsabilidad

al igual que han hecho todas las instituciones públicas todas las instituciones públicas es evidente que se han podido cometer errores administrativos

es evidente que cuando se han podido producir nuestra actitud la actitud del gobierno vasco ha sido siempre tratar de corregirlos y evitar que se vuelvan a reproducir o a producir no nos hemos ocultado

asumimos la necesidad de seguir mejorando los procedimientos administrativos y de control ahora bien como he dicho en otras ocasiones solicitamos prudencia y ponderación en las críticas y acusaciones porque en ningún momento se ha detectado ningún tipo de actuación ilícita en todo caso

reitero del parlamento el tribunal vasco de cuentas públicas y la comisión del código ético estamos dispuestos a ofrecer toda la información y a adoptar

pero no aceptamos que se cuestione la transparencia y el rigor de la institución utilizando información sesgada medias verdades y acusaciones sin fundamento

señor urruzuno la representatividad de la opinión de la realidad social herri baten taupada arrakasta la representatividad de la realidad social no es patrimonio de euskal herria bildu

ni siquiera de la mayoría una huelga que pretendía ser general y cuyo resultado no voy a calificar no les da patente de corso para arrogarse plantear demandas en nombre del conjunto de la sociedad vasca reitero lo que he dicho en euskera todo mi respeto a las personas que participaron en el llamamiento a la huelga general pero con el mismo respeto podría decirle que las personas que no secundaron la huelga general fueron muchas más fueron la inmensa mayoría hubo y hay muchas más razones para no hacer huelga que para convocarla de hecho respondí por escrito sí señor urruzuno respondí por escrito a una carta

en representación de la carta de derechos sociales de euskal herria yo respondí y respondí por escrito y punto por punto a todas las razones de la llamada tabla reivindicativa

que ya estaba registrada los convocantes de una huelga que considero totalmente desproporcionada y desenfocada y no he pasado de esa calificación esto ha sido evidente además de la clara intencionalidad política de la convocatoria

en reconocer que es preciso mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y especialmente de la juventud que es preciso derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral señor urruzuno

en el congreso de los diputados soy el primero en reconocer que es preciso trabajar desde la política para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones ahora bien ustedes podían haber planteado y negociado todas estas reivindicaciones en el momento de la conformación del nuevo gobierno español con quien procede con quien procede con quien procede también las cuestiones de estado las cuestiones de estado que afectan a euskadi pero no lo han hecho no lo han hecho

aquí huelga general y en madrid cheque en blanco para el gobierno español

rechazan la mesa de diálogo social con los logros que la consejera san josé ha mencionado anteriormente una mesa de diálogo social que yo impulsé e incluso respondiendo a preguntas de su grupo parlamentario

en relación a la controversia que se suscitó por un determinado acuerdo

no ha subido el salario mínimo interprofesional hasta los mil doscientos euros que usted reclama aquí por cierto tratándose de ayudas

implementar medidas en este sentido podría hacerlo cuando regalaron sus votos en madrid

ni de los trabajadores ni de los parados ni del marco vasco de relaciones laborales

a ver por partes a ver si consigo aclarar tu nahasmena

del señor erkorekaa a madrid me recuerda a la visita que hago al banco que lo único de regalo que me dan es un calendario

el señor erkoreka que cada vez va a madrid le da un calendario bueno pues si es lo que ustedes han solicitado ayer en la iniciativa legislativa es lo que ustedes han solicitado entonces puede usted referir al señor erkoreka cuando son ustedes los que lo han solicitado y cuando son ustedes los que según ustedes es patrimonio de lo que aquí se ha acordado señor urruzuno sea coherente aurrenekoa naiz

satisfacer determinados protagonismos instrumentalizar las reivindicaciones y la buena fe de las personas preocupadas por sus pensiones de acuerdo pero en la práctica qué aspectos positivos y concretos se han alcanzado

es más de lo mismo más de lo mismo no lo entiendo

buenos días gracias presidenta lehendakari consejeros consejeras señorías

estos últimos años hemos recibido un montón de informes de documentos de toda índole desde la secretaría de

más largos más cortos muchos pero esta vez ha sido a través de los medios de comunicación

hizo público el anuncio de la propuesta al gobierno de pedro sánchez en relación con el acercamiento al país vasco de más de doscientos presos de eta y

de la política penitenciaria en nuestras cárceles y en las de nuestro entorno además o sea en relación con el plan

sin arrepentimiento sin colaboración con la justicia y sin dar ningún paso en itinerarios de reinserción el planteamiento

es el reagrupamiento del colectivo criminal

consejero qué razones han llevado al ejecutivo que preside a solicitar el reagrupamiento de los presos de eta muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor barrio por el momento todavía sigo siendo lehendakari algo más que consejero

el gobierno vasco ha propuesto antes y ahora el acercamiento a cárceles cercanas a su entorno familiar antes y ahora una propuesta alineada con la legalidad penitenciara y constitucional y que está comprometida en nuestro programa de gobierno

ubicados a menos de doscientos cincuenta kilómetros de euskadi en octubre del año dos mil dieciocho entregué esta misma propuesta al presidente pedro sánchez

se ha reducido en un veinte por ciento aproximadamente y ahora quedan en torno

en este marco la actualización de aquella propuesta plantea preparar la reubicación en siete centros

yo no hablo de reagrupamiento y no me confundo con los conceptos señor barrio usted me pregunta por las razones para plantear esta propuesta y le citaré cinco la plena confirmación

y definitiva de eta la disminución sustancial del número total de presos vinculados a eta la constatación de que el alejamiento no el alejamiento no incentiva la reinserción el alejamiento no incentiva la reinserción

la cada vez mayor incomprensión de la sociedad vasca en relación con el mantenimiento de las políticas de alejamiento

y el hecho de que adoptar esta decisión significa cumplir la ley señor barrio más en concreto cumplir lo previsto en el artículo doce punto uno de la ley orgánica

el acercamiento y por otro considera que el reconocimiento del daño injusto provocado es un paso necesario en los procesos de reinserción eskerrik asko

gracias señor lehendakari usted sabe que cumplir la ley es lo que está haciendo

lo que están haciendo los gobiernos en relación con la dispersión no le tengo que recordar el aval de la dispersión al tribunal

lo tiene que tener usted claro señor lehendakari vamos a ver este es un plan del para que nos aclare es un plan del gobierno vasco es un plan suyo

del pnv porque su socio de gobierno en relación con el plan que fue publicado recientemente su socio de gobierno no conocía este plan que van ustedes a trasladar al presidente sánchez no lo conocía además dijo que había estudiado que no lo conocía de quién es este plan efectivamente no porque el plan es nuevo es nuevo por la dimensión del mismo y por la propuesta no solo de acercamiento y vuelvo a decir es que lo he empleado porque sí el de reagrupamiento de los miembros de la banda en un en pequeño grupo de cárceles de cerca de cuarenta a siete eso es un plan de reagrupamiento de un colectivo que no se ha desmarcado de la historia criminal de la banda terrorista y que funciona además como un colectivo unitario y organizado porque eso es así ese grupo de criminales unidos

eso lo sabe eso lo sabe la policía y así lo ha dicho

tiene que tener una consideración también en sus planes no ese grupo de criminales unidos adquiere

y que lideran además ese colectivo o sea ese agrupamiento es peligroso en sí mismo

no han asumido que matar inocentes estuvo mal y no han colaborado con la justicia en crímenes sin resolver de los comandos a los que pertenecían

más importantes de víctimas del terrorismo en relación con esa cuestión mire yo creo que estamos en una rentabilidad electoral señor lehendakari es decir son ustedes insaciable lehendakari en el partido nacionalista vasco a por el voto de la izquierda abertzale a por el voto estamos en precampaña electoral

donde navegar en el caladero de bildu en este momento pues los presos de eta pues venga

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor barrio créame si

en todo caso usted habla de reagrupamiento disolución alejamiento acercamiento y mezcla los conceptos como también lo dije en una nota publicada hace quince días yo le invito a usted a pensar

no ya solo en las consideraciones que el propio señor aznar podría hacer

sino también en la reflexión sobre qué ha traído el alejamiento

alguna incidencia en el cambio de estrategia de las personas en las cárceles mire ustedes no hacen más que proclamar el imperio de la ley pues bien ni la ley ni ninguna sentencia establece el alejamiento como parte de la pena al contrario la ley dice que en la medida de lo posible los presos debe ubicarse en cárceles cercanas a su entorno social

necesita actualizar su enfoque y lo que estamos proponiendo es lo mismo que ha hecho el gobierno francés con el apoyo de las asociaciones de víctimas del terrorismo

sino como una medida para aliviar una situación injusta para las familias y para favorecer los procesos legales de reinserción

cuando cuenta con el pleno respaldo legal y es una cuestión de humanidad eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera

muchas gracias señora presidenta lehendakari miembros del gobierno señorías buenos días a todos señor lehendakari el pasado diciembre la sección segunda de la audiencia provincial de álava dictó una sentencia que usted estoy seguro que conoce bien la trescientos cinco barra dos mil diecinueve que ponía fin de momento al

no el primero por desgracia pero sí el mayor y más grande que afecta de lleno a altos cargos de la administración puestos designados por el partido nacionalista vasco y altos cargos

repite una consideración en varias ocasiones y esa consideración y especialmente lo hace cuando habla de los hechos en los que fundamenta

dice que fueron altos cargos del partido nacionalista vasco quienes decidieron entre ellos montar un entramado de empresas

para que aprovechándose de los contactos políticos y de la ascendencia política que tenían sobre otros miembros del partido nacionalista vasco

ocupaban en administraciones públicas y de las relaciones con otros cargos del partido nacionalista vasco en distintas instituciones amañar contratos y conseguir

la sentencia por eso yo le pregunto lehendakari qué responsabilidades políticas por estos hechos va a asumir el partido nacionalista vasco durante todos estos años hemos estado oyendo que

que no era el lehendakari entonces pero entonces sí presidía el partido nacionalista vasco y se lo digo porque desde que se conocieron estos hechos se iniciaron diversas

de álava en las que su partido trato de torpedear la acción de esas comisiones de investigación en la que su partido votó siempre en contra de las conclusiones de esas comisiones de investigación hechos que son perfectamente claros y avalados en estos momentos

que todos conocemos porque esos hechos eran ciertos eso yo entiendo que tiene una responsabilidad política a

que han sido condenadas a penas muy severas y todos aquellos cargos presidentes de cuadrillas alcaldes que participaron en aquellos hechos

descolgaron el teléfono y llamaron a sabin etxea para decir aquí está pasando algo aquí se están cometiendo delitos mi opinión personal señor lehendakari es porque ellos pensaban que ese era el funcionamiento

lehendakari quién y cuándo va a asumir responsabilidades políticas sobre estos hechos tan graves que han manchado todas nuestras instituciones más allá
de que usted haya pedido perdón gracias eskerrik asko ruiz de arbulo jauna lehendakari jauna zurea da hitza

por lo que represento y tengo que hacer referencia a que mi postura en este caso ha sido conocida desde el primer día la hice pública cuando

solo dos semanas después de conocerse este caso la reiteré a finales del año pasado el día diecisiete de diciembre nada más conocerse la sentencia el día veinticuatro de diciembre en un artículo publicado y el día veintisiete de diciembre en el acto de recepción

yo reitero hoy como respuesta a su pregunta repruebo todo caso de corrupción

es total y este es un principio básico y lo considero un deber público mi responsabilidad en aquel momento fue actuar desde el primer día con celeridad claridad y contundencia y en aquel momento no era lo habitual y lo hicimos y lo hemos mantenido hasta hoy y lo mantendremos en aquel momento y siempre me ha preocupado me preocupaba me sigue preocupando la interpretación de que la actuación

de unas personas concretas por muy altos cargos que fueran algunas de esas personas pudiera vincularse a la actuación de un partido político con una trayectoria

mi responsabilidad nuestra responsabilidad es aceptar lo que dicen los tribunales y reiterar lo que dice esa sentencia aunque no sea firme lo que dice esa sentencia aunque no sea firme se trata de comportamientos particulares mi responsabilidad pública ha sido reprobar esta actitud

del partido nacionalista vasco con más de treinta casos de corrupción con sentencias ya casi todas firmes ya no es tan intachable ya no son sí

esa trayectoria no es tan intachable y el compromiso de transparencia no es tan intachable personas que estuvieron implicadas en aquel caso de miguel

el mismo modo de actuar los mismos departamentos de la administración las mismas administraciones y eso señor lehendakari

eso no ha cambiado y nosotros lo que necesitamos es que usted de un paso adelante yo no pongo en duda su honradez pero me gustaría que quedara limpia la imagen de las instituciones vascas de las diputaciones forales del gobierno vasco que miembros de su partido
han manchado con la podredumbre y la corrupción eskerrik asko ruiz de arbulo jauna lehendakari jauna zurea da hitza

por lo que son casos absolutamente diferentes antes ha hablado de mordidas y ahora hace referencia

entonces estamos enredando y yo le recuerdo que he solicitado disculpas a la sociedad por una actitud

respetemos a la justicia que usted tanto invoca señor ruiz de arbulo respetemos a las personas a todas a todas también a las once que han sufrido un calvario a lo largo de diez años y han terminado siendo absueltas de toda responsabilidad las personas señor ruiz de arbulo respetemos los derechos laborales también de las personas mientras no exista una sentencia firme que cuestione estos derechos respetemos a la justicia y le repito lo que dice la sentencia nos encontramos ante comportamientos individuales lo afirmó la fiscalía

y la propia sentencia concluye que no existe vínculo alguno entre ese comportamiento individual y la responsabilidad de ningún partido político ni institución

desde el primer día hace casi diez años se adoptaron las medidas cautelares necesarias para apartar a las personas hoy condenadas

también de toda responsabilidad interna en el partido nacionalista vasco en el caso de que la tuvieran cuya presidencia

un partido que tenía en aquel momento sus estatutos sus procedimientos

todos ellos a raíz de aquellos hechos y esto es actuar con responsabilidad política y pública desde el primer momento desde el punto de vista de la responsabilidad del gobierno los servicios jurídicos han estado personados en la causa desde el primer día

y restituir el daño económico que se haya podido causar a la hacienda general del país vasco y ese va a seguir siendo nuestro compromiso con todas las palabras eskerrik asko

según lo que he escuchado no me queda claro aún quién decide los contratos a dedo en gobierno vasco

eskerrik asko legebiltzarburu andrea no se preocupe señora macazaga a mí no me aburre y

la única directriz que sigue el gobierno vasco en su actuación contractual es la aplicación de la normativa vigente en materia de contratación pública eskerrik asko eskerrik asko

de que el gobierno vasco está siguiendo la misma estrategia que diseñó con el fraude de las ope dopadas

los contratos a dedo del grupo montai han saltado a la opinión pública por la sospecha que suscita pensar que son parte de otra red clientelar de su partido

encargan a un miembro del pnv hacer un informe sobre un proveedor del pnv cuyo administrador único es el pnv sus trabajadores son cargos públicos del pnv

a los departamentos del gobierno del pnv solo faltaría que fuera sesgado y lo es señor lehendakari

muchos contratos que adelgazan el montante ustedes mismos nos los han facilitado mediante mi solicitud de información y sin embargo no aparecen en el informe de la oce

y dónde está el rigor y la transparencia cuando en su portal de transparencia

ni la mitad de las facturas de gogora ninguna factura de

a esto le llama usted rigor y transparencia señor lehendakari de momento no nos está dando confianza ni es usted creíble si lo que dice no se ajusta a la realidad de momento todo hace sospechar que existe

que parece es quien decide a quién se contrata en su gobierno de nuevo nos encontramos que en euskadi para tener oportunidad hay que tener un carné

cómo puede ser que una empresa del grupo montai que es contratada para coordinar plaza gogora como es denok tenga la capacidad de decidir

o el aire acondicionado y que siempre sean las empresas del grupo de aitor elorza

troceando contratos porque el decreto que usted aquí ha mencionado lleva vigente dos días no siete años la suma de todos sus contratos partidos superan con creces

también por cierto hay contratos únicos que superan dicha cantidad es decir vulneran la ley hay contratos por el mismo trabajo que en la ley anterior costaban dieciocho mil euros más iva

por no hablar de los precios estratosféricos de la empresa montai precios que suponen un sobrecoste

lo sufre el erario público no sé en beneficio de quién señor lehendakari montai una empresa cuyo objeto es la organización de eventos tiene un buen chollo con ustedes

en el que puede encontrar de todo tan pronto les dota de carpas casi siempre subcontratadas que les dota de colchones carnés aire acondicionado o cámaras con trípode incluso arregla ordenadores tiene usted un chollo

señor lehendakari tenemos elementos suficientes que evidencian que las cosas no se han hecho bien taparlo

ni el antídoto para luchar contra el clientelismo si usted no destapa tendremos que ser otros quien levantemos el velo
no vale todo con pedir perdón mila esker eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora macazaga con absoluta tranquilidad la única directriz que sigue el gobierno reitero

en el caso de los contratos menores lo que usted denomina contratación directa la contratación del gobierno vasco se limita a aplicar la normativa vigente y así ha quedado acreditado en el informe de la oficina de control económico al que he hecho mención anteriormente y he reconocido y lo reitero la existencia de alguna deficiencia

la aplicación de la normativa legal no se ha cuestionado de ningún modo y como he dicho con anterioridad el real decreto ley

lo ratifica con mayor rotundidad en ningún caso se puede hablar de ilegalidad

acceso a dicho informe y habrá podido constatar las contradicciones interpretativas que se han generado con ocasión de la aplicación de la normativa con respecto a los contratos menores la oficina de control económico a la vista de las últimas normas y dictámenes publicados

unas recomendaciones que insisto vamos a analizar para su aplicación al conjunto de la administración pública le diré más

se han visto ratificadas por la reciente modificación de la regulación de los contratos menores y esta modificación ha sido motivada por razones de seguridad jurídica para solucionar los graves problemas técnicos de la regulación vigente hasta hoy mismo por cierto haciendo referencia a la oficina de control económico

de sospecha de manera que también en ese sentido se ha escrito en los medios de comunicación ha puesto en duda al director de la oficina de control económico

y le diré que en la redacción del informe ha intervenido personal funcionario público personal funcionario público de los servicios de intervención auditoría

es también funcionario de carrera y titular

desde hace treinta años funcionario de carrera titular del puesto de responsable de intervención y nunca nunca ha

el gobierno ha tomado la iniciativa y hemos asumido la necesidad de la mejora continua y es voluntad de este gobierno analizar y poner en marcha la aplicación de las mejoras en la contratación pública

he reconocido públicamente la existencia de un margen de mejora en el desarrollo de la actuación contractual de esta administración me consta

extender a todas las instituciones públicas a todas las instituciones públicas incluidas las europeas nadie es perfecto ninguna institución pública es perfecta a la hora de contratar como puede apreciarse claramente en los informes de los tribunales de cuentas públicas beraz

buenos días gracias señora presidenta señor lehendakari consejeros señorías señora consejera le interpelo

bueno que pasaron en nuestra comunidad autónoma a primeros del mes de diciembre del pasado dos mil diecinueve cuando teníamos conocimiento que el centro de microbiología

a los tres días de esta confirmación supimos que el hombre infectado por rabia había fallecido estaba bueno bastante

el avanzado estado de la enfermedad hizo imposible su recuperación tal y como se temía y que la lesión

era tarde para evitar el fallecimiento ante esta infección actuar con rapidez es fundamental los protocolos son lo que

el hombre fallecido en cruces fue violentamente atacado por un gato

es endémica infecciones que se consideraban erradicadas o al menos controladas están repuntando debido a la mayor movilidad

prevalente particularmente en el medio rural en nuestra comunidad autónoma las administraciones competentes en materia sanitaria animal

tres diputaciones forales y responsables de que se cumpla la legislación

autónoma vasca recuerdo perfectamente cuando en los pueblos se nos avisaba para la vacunación se nos pasaba el día la hora propuesto para la vacunación de los perros la vacunación

porque era algo muy interiorizado y que nos daba muchísima seguridad y tranquilidad porque la rabia es una enfermedad que ha dejado secuela

o lo han padecido en el entorno nadie faltaba esta llegada del veterinario además contribuía a revisar el animal en general y hacer un control de su salud

junto con cataluña y galicia son las comunidades autónomas donde no es legalmente obligatorio vacunar contra la rabia

sí es obligatorio en otros países de europa excepto creo que francia y bélgica no es obligatorio pero en otros sí

que se aplica a las enfermedades humanas en las que las enfermedades consideradas erradicadas están repuntando precisamente por rebajar los niveles de vacunación

censados están vacunados la organización mundial de la salud recomienda que al menos un setenta por ciento de la población canina debe estar vacunada

objetiva estamos hablando de un problema de salud pública no podemos olvidar que la rabia es también una enfermedad mortal para los humanos

además de los perros están como decíamos antes hasta hace poco que era el animal de compañía más común pero también está el gato

está el murciélago que puede morder también a otros animales está el hurón ante el hecho del fallecimiento de la persona en barakaldo por rabia

lo siguiente el protocolo de vigilancia epidemiológico de osakidetza destaca que aunque este caso es un caso aislado

procedentes de países endémicos a consecuencia de la falta de información este hecho nos debe hacer llamar la atención a mí me llamó mucho la atención

por escrito y que no dijera nada más eso me llamó la atención porque creo que hay que informar

hay que hacer un protocolo de información y yo en este caso no lo he visto decía el catedrático del área de sanidad animal de la facultad de veterinaria de la universidad del ceu también

y también en la academia veterinaria de murcia

emergente a nivel mundial debido a la aparición de nuevas variables del virus

y debido a la entrada también de animales menores de tres meses sin vacunar que proceden de países de la unión europea y terceros con rabia endémica práctica cada vez más habitual

a este hecho se une el intenso tráfico de personas y animales que continuamente pasan y se mueven por nuestro país y por todo el territorio europeo nuestra comunidad autónoma

que comunica con el norte de áfrica y europa somos territorio que acogemos a gentes de todo el mundo hay una movilidad

de personas muy amplia con costumbres y hábitos muy diferentes nosotros tenemos unos conceptos de lo que es la sanidad y la higiene que probablemente no todo el mundo lo tiene no por nada sino porque son sus hábitos y costumbres no en españa

estas nuevas variantes pueden transmitirse y producir cuadros de rabia tanto en sus animales de compañía como en humanos dando lugar a cuadros indistinguibles clínicamente de la producida por el virus clásico esto hace que los esfuerzos para eliminar la infección en animales domésticos se haya complicado de forma importante y que la vacunación de las mascotas cobra más importancia aún si cabe como le decía esto no lo décimos desde el grupo popular esto lo decía

experto y que participa en muchísimos foros como importante experto que yo supongo que no tiene el interés de alarmar y digo esto porque

a la portavoz del grupo popular que fue la proponente de una moción

poniendo encima de la mesa una realidad y queremos

nuestro grupo quiere saber señora consejera cuál es el propósito del gobierno ante la petición que ya se anunció por el colegio de veterinarios del país vasco

sea obligatoria en el país vasco nos gustaría saber he podido leer en alguna información

a esgrimir razones económicas para que no sea obligatoria en el país vasco la vacuna antirrábica y me gustaría saber si el gobierno también comparte este criterio y si lo comparte si podría explicarnos cuáles son esas razones

acertamos a entender hay un dato que me gustaría

la fuente mundial más importante de la rabia en los seres humanos viene a través

de rabia no controlada en los perros y también

hablaban en algún sitio dice bueno hay que poner también registros de otros animales pero hay un dato que es que el noventa y nueve por ciento de los casos se produce por mordedura de perros o sea que sí que hay otros animales pero

y de ahí entendemos la importancia de cumplir la normativa que nos hemos dotado porque aparte de la vacuna sí o no aquí tenemos un decreto una ley de

y que regula la tenencia de animales y señora consejera existen problemas con los registros no funcionan bien

así lo dice la ley y me gustaría saber

que ese decreto contempla si está actuando porque ustedes

en juntas generales de álava presentaron como enmienda a la iniciativa del grupo popular y que fue lo que se aprobó crear una mesa de trabajo

instituciones competentes gobierno vasco y diputaciones y técnicos en la materia pero es que esta mesa de seguimiento es eso son

incorporar según la temática a expertos con lo cual yo me he quedado descolocada si tenemos una mesa

teníamos entendido que el criterio del gobierno es reducir los órganos porque hay demasiados órganos de participación y control y teniendo una mesa ustedes proponen crear otra mesa y me gustaría que me aclare este término porque no termino de entenderlo

evidentemente ha sido prolija y no tengo nada más que añadir al respecto sí me gustaría señalar que en euskadi llevamos

y no han existido ni casos ni sospechas a esta enfermedad ni casos ni sospechas la situación epidemiológica de euskadi no ha variado

se estableció que no fuera obligatoria es decir desde aquel momento estamos en la misma absoluta situación sin ningún caso y

de zorros murciélagos a los que usted también hacía referencia tampoco ha existido ningún caso ni ninguna

y anualmente en euskadi se vacuna de manera voluntaria aproximadamente los datos de los que disponemos nosotros son alrededor de un cuarenta por ciento del censo canino y es cierto que las comunidades autónomas limítrofes de euskadi tanto navarra como la rioja castilla león y cantabria sí proceden a una vacunación obligatoria pero también hemos analizado qué es lo que ocurre

y hemos mantenido diversos contactos con veterinarios en el ámbito

y de forma general no se vacuna tampoco allí de forma obligatoria y por tanto tenemos dos situaciones realmente diferentes

vacunación obligatoria a nivel estatal tampoco las comunidades autónomas disponemos de un establecimiento una ley ni

a realizar determinadas actuaciones es decir no existe por parte del ministerio de agricultura ninguna pauta única que nos obligue a la vacunación

de la misma si analizamos el censo canino en euskadi se encuentra controlado registrado

que depende de la dirección de agricultura y ganadería del gobierno vasco y además

provenientes de europa y de áfrica que son nuestras dos zonas limítrofes siendo el estado español también europa pero décimos

con francia con iparralde que atraviesan euskadi en verano sí se ha hecho también un análisis específico y se observa que los viajeros con origen y destino hacia marruecos y otros países de áfrica viajan

de viajeros que vayan con animales o más cotas realmente y además perros susceptibles de transmitir la enfermedad desde luego son escasos o nulos este tipo de viaje con mascotas está mucho más centrado en aquellos que vienen del norte o del centro de europa sin embargo sí es cierto que aquellos

de áfrica como el caso que usted comentaba que viene de marruecos pueden traer

enfermedad si analizamos también lo que ha ocurrido en el estado español

solamente ha habido un caso de rabia solamente uno por tanto también tenemos que considerar qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en todo el estado para

actuación sin embargo somos conscientes de que la preocupación del colegio de veterinarios del país vasco nos va transmitiendo cada vez una alerta mayor y no voy a hablar de alarma voy a hablar de alerta

porque todavía como usted bien decía hay muchas zonas en las que la enfermedad es endémica y en estos momentos se está produciendo mucho tránsito de viajeros y cada vez más que pueden o ellos mismos traer la enfermedad pero sobre todo pueden venir con animales que quizá a pesar

no se estén llevando a cabo de la forma adecuada por tanto lo que en este momento nos estamos planteando

criterio de las comunidades autónomas que están vacunando de forma obligatoria no existe un criterio único decía por parte del ministerio y tenemos también los criterios de lo que es el estado francés pero al mismo tiempo

lo que proponemos es que hagamos un análisis muy específico teniendo en cuenta todas las nuevas situaciones que se puede estar produciendo los datos de los que disponemos tanto gobierno vasco como diputaciones con todos los técnicos correspondientes pero de forma específica con el colegio de veterinarios del país vasco que nos permita adoptar una decisión no solo en este momento que a pesar de esa alerta no tenemos ni sospechas

de aquí a los próximos años que puede ser el establecimiento de una vacunación obligatoria y por supuesto si así se considera lo haremos y no estamos analizando ningún tipo de variable económica en este caso estamos hablando solamente

estamos colaborando también estrechamente con el departamento de salud desde el punto de vista de salud pública y tratamos de establecer quiero insistir de una forma rigurosa los criterios que nos permitan trabajar de aquí

con las instituciones competentes pero también atendiendo a ese colectivo que entendemos que son expertos que tienen datos diferentes a los que nosotros manejamos y a los que queremos escuchar y atender
de una forma específica e insisto rigurosa eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea lópez de ocariz andrea zurea da hitza

gracias señora consejera efectivamente nosotros tampoco nos cerramos solo a la vacunación obligatoria yo tengo

la vacunación obligatoria y créame que nos daba mucha tranquilidad y de hecho

nos da mucha tranquilidad pero es que aunque la vacunación sea voluntaria

informar por una cosa muy sencilla si aquí tenemos un perro pero no tengo no sé en qué comunidades autónomas es obligatorio si yo me traslado con ese perro sin vacunar a esa comunidad estoy ilegal ese hecho es así a cualquier sitio que me traslade por lo tanto creo que hay veces que bueno pues regalo un perro pero es que a quien se le regala el perro

las obligaciones y cómo hay que registrarlo

pues no funciona eso lo sabemos hace mucho tiempo los ayuntamientos alguien da de alta pero luego no sabemos si se lo han dado de baja si ha muerto si lo ha cambiado si se ha ido si

con algunos datos pero hoy está muy lejos de lo que el decreto como le decía el decreto dos mil cuatro exige y nosotros creemos que

hace mucha función de seguimiento porque a los ayuntamientos no llega nada no se encuentran en muchos casos muy indefensos no porque el artículo dos

tiene dificultades para tener datos actualizados hay datos pero hay datos que no se sabe muy bien y las altas que tienen no sabemos si han fallecido o no luego las obligaciones del propietario como le decía sabe el propietario de un perro cuál es la obligación

si tiene que ir al ayuntamiento a registrarse qué tiene que hacer ante una agresión por ejemplo que produzca

hay mucho trabajo por hacer no solo la vacunación que eso bueno creo que con equipos de expertos y con datos se puede ir avanzando pero también hay que decir lo que pasa igual la vacunación voluntaria

creo que tenemos un campo de trabajo importante y que en este momento tanto el cumplimiento de la ley como el decreto que

tiene un cumplimiento muy bajo y creo que necesita medidas para activar todos esos controles que nos hemos dado también hay sanciones pero

ni para vigilar quiero decir que hay obligaciones pero no hay medios

y que también yo creo que desde el área de salud se debe de incorporar ciertos datos

esta información que debe haber también creemos que debe haber una coordinación con el departamento de salud para determinados protocolos

información más visible más visual que lo que pueda figurar en un decreto para que

ante las agresiones dónde acudir cómo acudir por lo tanto señora consejera nosotros con ánimo constructivo presentaremos una moción para profundizar un poco más
en estos aspectos que creemos que hoy están débiles nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

señora lópez de ocariz por empezar por el final le agradezco el tono constructivo

estoy de acuerdo con usted que en muchas ocasiones no solamente la vacunación que bueno quizá algunos propietarios estemos más concienciados que otros pero sí es cierto que en muchas ocasiones

los perros como animales de compañía y no siempre con una responsabilidad adecuada por tanto sí es cierto que el tema de la sensibilización y el tema de la información

simplemente de modos de comportamiento como en este caso que estamos hablando de la rabia como el de la vacunación por tanto

vamos a asumirlo como un reto relevante y vamos a trabajarlo de forma consensuada eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako

en la propuesta que presentaron ustedes el señor rementeria y usted se la voy a mostrar esta propuesta

ustedes planteaban no una línea cinco de metro como se había pedido insistentemente desde nuestro grupo y desde otros grupos sino el desvío de la línea de euskotren

por las afueras de galdakao desviarla desde etxebarri o desde basauri

hay cuestiones de esa propuesta que son interesantes es interesante que usted nos aclare y de ahí el objeto de esta interpelación porque

es el que necesita galdakao es el que necesita la comarca o no nuestro grupo y otros grupos siempre hemos defendido que la línea cinco de metro era lo mejor pero bueno ustedes defienden el desvío de la línea de euskotren y entonces lo que tenemos que ver es si ese desvío

que a día de hoy tiene ese municipio y esa comarca en primer lugar está la conexión de ese posible desvío

con el metro que llega hasta etxebarri y con la línea tres de metro que pasa por san antonio también y va

se va a mantener la construcción de la intermodal de sarratu

es que en la propuesta en la declaración de intenciones que presentaron ustedes en dos mil diecinueve recogen solo dos paradas la de galdakao y la del hospital de galdakao

dos barrios como bengoetxe y aperribai que en su momento sí estaban tenían servicio del proyecto de línea cinco de metro

van a tener algún servicio a través de una parada específica sí o no la tercera cuestión es las fases del proyecto

y una segunda fase entre galdakao y sarratu realmente

por el montante del proyecto es necesario hacerlo en dos fases no se puede hacer en única fase que dé respuesta y dé solución desde el principio porque

de retraso más lo que le podamos sumar a la realización del proyecto más que encuentren ustedes dinero y la oportunidad de hacerlo y que no haya elecciones por medio nos podemos ir a otros quince veinte años y si nos quedamos en la primera fase y no hacemos la segunda

qué solución es esa no de hecho de hecho en galdakao uno de los principales problemas

que tienen que utilizar desde galdakao hasta etxebarri dónde paran dónde no paran

y luego por otra parte está una cuestión que es accesoria pero no menos importante para el desarrollo de esa comarca y es si ustedes desvían la línea de euskotren qué pasa con la línea que se queda en desuso si es que se queda en desuso

y luego tiene en ariz junto con una playa de vías basauri en su momento

ha puesto los ojos en esa zona para un posible desarrollo urbanístico desde luego el paso a nivel

y la cuestión es si se van a abordar esas actuaciones junto con un posible proyecto de línea o de desvío de euskotren o no

el compromiso tanto de la diputación foral de bizkaia como del gobierno vasco al ocuparse del cincuenta por ciento

en metro bilbao es un compromiso desde luego que ha ido materializándose a lo largo de los años y que ha constituido

de las cuales todavía nos quedan por abonar doscientos ochenta y dos millónes además en cuanto a la línea tres que ha sido hoy denominada línea tres pero que también ha sido

nadie duda que la línea tres es un servicio de metro a pesar de que se esté dando sobre una mejora y una adaptación de una línea de euskotren también han sido muy relevantes y además

a día de hoy desde luego están siendo un éxito que es innegable y en esa línea queremos continuar por eso hacíamos esa referencia y en ese sentido fue el compromiso que adquirimos y desde luego a partir de lo que hablamos también en esta cámara y de

así como con los ayuntamientos concernientes se empezó a redactar un nuevo estudio informativo para una conexión ferroviaria que uniera el hospital de usansolo denominada línea cinco o como ustedes quieran y que se encargó en el primer semestre de dos mil diecinueve pero teniendo en cuenta sobre todo eso que pretendíamos unir líneas ya existentes es decir la línea tres desarrollada como usted mencionaba

durangaldea con su hospital de referencia que es el hospital de galdakao la asistencia técnica comenzó su trabajo en agosto de dos mil diecinueve y prevé un trabajo de doce meses cuál es el objetivo

estructurar también el territorio de bizkaia y no solamente

una línea cinco de metro que llega a galdakao sino que seamos capaces de llegar a galdakao conectar con el hospital y conectar con todo durangaldea ese es el objetivo de este nuevo estudio informativo captando el mayor número de viajeros posible y dando el mejor servicio posible sea la línea del color que sea

y los servicios adecuados en este momento estamos trabajando sobre un abanico de diferentes alternativas diferentes soluciones pero

qué está siendo el resultado si bien en esa presentación con el diputado general de bizkaia abogábamos porque

fuera la conexión desde durango hasta el hospital porque dábamos servicio ese hospital y sabíamos y sabemos a día de hoy que está siendo problemático la llegada la cantidad de vehículos privados que se mueven por ahí

de lo que supondría realizar esa primera fase nos lleva a decir que tendríamos una penalización importante en cuanto a tiempos para aquellos viajeros para aquellas personas residentes en galdakao que quisieran llegar a bilbao porque tendrían que ir hacia tendrían que retrasar ir hacia deba y volver el carril principal y además se genera un tráfico que puede dar lugar a problemas

es una vía única y que puede poner en duda las frecuencias que pretendemos dar por tanto si analizamos esa situación junto con que estaríamos produciendo un tráfico muy importante en la zona de basauri como usted ya estaba haciendo referencia

que no parece lo más adecuado empezar por esa fase por tanto lo que nos estamos planteando y espero que el estudio informativo dé muchísimos más detalles y mucho más en rigor que empezaríamos justo

aztertzen ari garela y finalmente un único detalle me decía usted que quizá por el montante económico

fase uno y fase dos la verdad es que es un montante muy importante entre cuatrocientos y quinientos millónes de euros

realizarlo en dos fases podía ser la solución más adecuada no obstante en esos seis meses que nos quedan todavía largos de trabajo que le quedan a la asistencia técnica iremos
resolviendo todas estas cuestiones eskerrik asko eskerrik asko

aunque lo sea usted me parecía injusto quedarme a medias en lo más interesante bueno yo señora tapia

me alegro de que hayan reconsiderado alguna de las cuestiones efectivamente como dice usted

teniendo en cuenta que en los habitantes de galdakao son treinta y dos mil personas o sea las personas que se beneficiarían de la fase dos son treinta y dos mil

darle la vuelta al proyecto me sorprende el coste

un coste en torno a ciento ochenta doscientos millónes pero bueno si se duplica igual tendríamos que ver un poco de dónde viene eso yo no sé porque no me ha mencionado si incluye actuaciones accesorias como los pasos a nivel y demás porque claro eso también es una cuestión muy importante ha mencionado usted que no tenemos que fijarnos en el color de la línea sino en el servicio y bueno yo puedo comprar esa idea siempre y cuando

y siempre y cuando el diseño de ese servicio sea el adecuado como usted ha dicho aperribai y bengoetxe aparecían en su momento y

y entonces eso es una cuestión muy importante porque

esta ley que presentan ustedes este proyecto de ley tiene unos buenos principios

la movilidad sostenible y la accesibilidad universal constituyen un derecho individual y colectivo es decir no tienen más derecho

los habitantes de galdakao centro que los de aperribai y bengoetxe obviamente las soluciones tendrán que ser diferentes en función del tamaño de población atendida

luego otra cuestión a la que no se ha referido pero sí me gustaría volver a insistirle es la cuestión de la intermodalidad de sarratu entiendo que no está

eliminar el tráfico y demás yo sobre sobre la cuestión del dinero y de lo que pueda retrasar esto el proyecto claro tengo que decirle que dentro de los principios que rigen el proyecto de ley de movilidad sostenible que usted nos presentó el otro día aparece la conciliación de transporte ferroviario como la

entiendo que actuaciones previas que haya tenido la diputación o incluso el gobierno no hayan atendido a este principio pero no entendería que no se atendiera hacia el futuro claro

ahora mismo dedicado al vehículo privado la diputación solo la diputación tiene seiscientos millónes de euros de inversión prevista doscientos para la supersur con cuatro kilómetros de servicio

tres kilómetros es decir que la diputación ahora mismo está poniendo por delante el vehículo privado antes que el ferrocarril y el transporte público

que los principios del proyecto de ley de movilidad sostenible se mantengan porque de cara al futuro entiendo que en cuanto a financiación la diputación

la misma prioridad no mayor prioridad todavía porque obviamente los principios de una ley vasca

presidente andrea señor becerra solamente aclarar el tema de sarratu evidente se está considerando que tenga la máxima intermodalidad porque de eso se trata

sobre una red ya existente pero que mejore los servicios y cuando hablaba de los colores

es un hecho que se ha construido de una forma diferente lo opera otro operador pero sin embargo los servicios son exactamente los mismos lo importante yo creo que tenemos que poner el acento ahí en las frecuencias los servicios la calidad las estaciones en definitiva todo aquello

como que estamos dentro de una línea que nos da una adecuada respuesta a nuestras necesidades y eso es lo que estamos trabajando en este caso también respecto

de durangaldea ese es el objetivo el presupuesto tómelo usted en este momento como

incipiente estamos todavía a mitad de estudio informativo esos son los números que aparecen en estos momentos pero hay que bajar

son los datos que nos está proporcionando en estos momentos y como usted bien dice

nuestra prioridad desde luego dotar del mejor servicio ferroviario a toda la comunidad autónoma de euskadi para que sea sobre la que construyamos nuestro sistema de movilidad

pero simplemente usted puede analizar lo que se trabajó creo que era

donde el propio diputado general habló de que en el dos mil veintiuno

esta línea por tanto creo que el compromiso está ahí y se demuestra con hechos eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera

yo creo que no voy a decir nada nuevo si vuelvo a repetir que la situación de las bodegas familiares y pequeñas de rioja alavesa

un grupo de pequeñas bodegas hace unos años pide crear una nueva denominación de origen y en eso

en una búsqueda de alternativas en una búsqueda de cómo llegar a final de mes cómo sobrevivir

dejando claro que son decisiones empresariales que para nada identitarias o es lo que a nuestro grupo le parece esa nueva denominación que se llama viñedos de álava arabako mahastiak solo es una solicitud a día de hoy y hay que decir que efectivamente aunque ha sido tarde el gobierno vasco ha tomado su bueno un poco en forma lenta pero sí que es verdad que ha dado sus pasos queremos mirar adelante

lo que en dos meses se nos va a presentar como probablemente alegaciones negativas en contra y después

allí también habrá dos meses como mínimo para poder

se podrá dar la resolución definitiva qué vamos a hacer como gobierno pues lo que hemos hecho hasta ahora dar el apoyo técnico y jurídico de acuerdo con todos nuestros técnicos

para que se resuelva de la forma más adecuada posible porque como usted bien dice

empresarial privada de una serie de bodegas a las que también nos toca defender tanto a los que se queden dentro de la denominación de origen calificada rioja

nuestro servicio va a ser exactamente igual igual de detallado igual de cuidadoso para hacerle seguir el camino que ellos consideren oportuno eskerrik asko

de usted pero también tengo que reconocer que en los diferentes agentes las diferentes posiciones son como poco curiosas

que se paró porque se confiaba en que el consejo regulador iba a actuar de buena fe de buena fe no actuó al contrario fue un desprecio un ataque y eso de que iba a

poner araba o a diferenciar rioja alavesa bueno pues fue un poco trampa diría yo y no se consiguió

por otro lado el gobierno de la rioja que dice que no hay que politizar este tema y lo politiza más que nadie porque va al ministerio a pedir que por favor esto se pare creo que se meten donde no les llaman

un poco lentas pero es verdad que las ha tomado y en ese sentido nos parece positivo pero sí que le pediría que bueno que su partido no sé si diría que el gobierno vasco o que el partido a nivel país vasco ha tomado sus decisiones toma unas cosas pero luego escuchamos al señor ramiro gonzález hablar y a mí como poco me crea dudas

de otra denominación habla de que es un error creo que también en este caso

está tergiversando el debate está tergiversando incluso la teoría y está diciendo que bueno que una denominación dentro de otra denominación es posible no es posible a día de hoy no es posible hay que ir al ministerio hay que cambiar la ley

entonces no tergiversemos quiero decir en este caso yo creo y eh bildu ayer lo dijo y hoy de nuevo lo vuelve a repetir creo que estamos en una misma trainera el señor urkullu lo ha dicho hoy por la mañana en una misma trainera estamos por la defensa de un modelo tradicional de bodegas familiares pequeñas que crean pueblos que crean comarca y eh bildu en eso se va a empeñar pero sí que pedimos una unidad de criterio una que entendemos que además la podemos compartir eskerrik asko

lo que le toca es trabajar con esas bodegas con todas las bodegas de rioja alavesa para defender

aquellas bodegas que han decidido promover y tratar de la denominación de origen calificada rioja con una nueva denominación de origen tendrán todo nuestro apoyo técnico y jurídico para que lo hagan de la mejor manera posible no obstante otro grupo de bodegas que quieren permanecer dentro de la denominación de origen calificada rioja y si desde luego eso es posible a través de crear una denominación propia de rioja alavesa diferenciada donde los caldos sean diferentes y donde se observen diferentes características como ocurre por ejemplo en la denominación de origen burdeos

es cierto tener que modificar una ley en el estado pero también nuestro soporte jurídico será si esa posibilidad es cierta y si desde luego

las dos mi opinión personal en este caso ni la opinión personal del gobierno del departamento creo que no es importante tenemos que trabajar y defender a los dos tipos de bodega

todo nuestro soporte para que sea un éxito tanto una como la otra eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera

gracias señora presidenta buenos días señora consejera

de la pregunta a finales del año dos mil dieciocho respondiendo a una interpelación que esta parlamentaria le dijo después de descartar definitivamente la línea cuatro del metro de bilbao anunció la realización de un estudio informativo completo para la solución de transporte ferroviario para los vecinos de rekalde e irala

de ese estudio anunció que se iba a llevar a cabo un proceso participativo con el fin de conocer cuál es la opción más adecuada sin embargo por lo que sabemos porque aquí

que no han sido convocados para intervenir en ese proceso informativo y además se suponía que se iba a elaborar durante todo el año dos mil diecinueve y que tiene que ser entregado en este año dos mil veinte y parece que

como le digo no se ha realizado por ello creemos necesario conocer cómo y de qué manera se va a articular ese proceso participativo que se prometió en su momento

hasta entonces con relación a la línea cuatro era replantearse cuál era la solución de transporte que iban a tener los vecinos de rekalde de irala

lo que se planteaban en todo caso es un servicio de características metro de calidad y con la frecuencia adecuada por ello queremos saber cuál es esa solución o cómo está

porque la señora llanos los ha citado pero sí es cierto que tal como le he comentado al señor becerra nuestro objetivo al replantear las dos líneas las dos alternativas tanto

línea cinco como la cuatro era tratar de utilizar los

para mejorándolos dar un servicio adecuado un servicio tipo metro con las frecuencias la calidad las estaciones adecuadas

además lo que nos planteamos era tratar de dar una solución a todo lo que era el sur de bilbao recalde irala sí pero que pudiéramos llegar a todo lo que es

en el centro de bilbao esa era la premisa con la que planteábamos el estudio informativo

es de nueve de mayo de dos mil diecinueve cuando se adjudica y se comienza a trabajar a partir de junio de dos mil diecinueve y tiene tres actuaciones distintas primero analizar todas las diferentes alternativas que se van a bueno poner

que se van a trabajar dentro de ese proceso participativo en segundo lugar el propio proceso participativo y con la solución o bueno con lo que se plantee dentro de ese proceso poder elaborar definitivamente el estudio informativo el primero de los análisis que es la de

son seis meses lo que conlleva ese proyecto y la verdad es que nos hemos alargado un poco más desde junio todavía no lo hemos finalizado porque estamos trabajando además sobre una línea que no es competencia de la comunidad autónoma que es competencia del estado pero bueno eso no es óbice para que continuemos en el desarrollo y esperamos finalizarlo desde luego para este mes

en dos meses pero también hemos considerado que lo vamos a alargar un poco más para dar cauce a todas las opiniones de todos los vecinos que no solamente son recalde e irala que queremos ampliarlo

lo hemos alargado seis meses más con el objetivo de que ese estudio informativo

y a todo lo que se nos plantee por parte de los vecinos también esa es la situación del proyecto a día de hoy eskerrik asko tapia andrea llanos andrea zurea da hitza

señora consejera yo le insisto en lo que le vengo diciendo siempre usted

con esta solución lo que está haciendo es primar

y en basauri tenemos transporte ferroviario y tenemos línea de metro sin embargo usted

puedan tener metro y sin embargo otros vecinos de bilbao no lo tengan

y además es que es posible que el metro llegue a bilbao lo que pasa es que ustedes han decidido que esos vecinos para ustedes no son una prioridad y que a la hora de invertir

y con el máximo respeto a los vecinos esto es como hacer un plato original y de nuevo o cocinar con sobras ustedes a los vecinos de rekalde lo que van a hacer es cocinar con sobras van a aprovechar las infraestructuras existentes y

una solución con la misma en condiciones similares de calidad y servicio porque además usted dijo que se vertebraba el territorio si se tenía un transporte en condiciones similares de calidad y servicio en este momento no lo tiene yo le reto

intente ir a basurto que está muy cerquita las vueltas que tiene que dar

de manera diferente y ahora me voy al proceso participativo

entonces que no es hacer al cien por ciento lo que digan los vecinos hombre no es hacer al cien por ciento pero tampoco al diez por ciento yo lo que sí le quiero solicitar

que todos los vecinos puedan opinar sobre el mismo sobre la solución dada sin embargo que tengan en cuenta lo que quieran los vecinos que no lo hagan como un simple paripé de ya les hemos dado audiencia pero luego nosotros hacemos lo que queramos yo creo que los vecinos de rekalde de irala del peñascal se merecen respeto se merecen no solo ser oídos sino ser escuchados y se merecen que la solución que se le dé que ya le digo es como cocinar con sobras que al menos sea una solución que de verdad vertebre el territorio

acaso la línea tres de metro es cocinar con sobras acaso no estamos dando un servicio cada cinco minutos

fantástica y con unas estaciones como las de la línea uno o las de la línea dos en algún momento he negado yo esa solución

sobre una línea existente con las mejoras necesarias para llegar a la zona alta y a la zona baja de irala

y eso significa tener que hacer una serie de obras y una serie de mejoras con el servicio y la frecuencia que pueden tener la línea uno y la línea dos y para nosotros toda la ciudadanía de euskadi todos tienen los mismos derechos pero también las mismas obligaciones y por tanto la solución que se va a plantear

para esos ciudadanos y ciudadanas y les escucharemos por eso estamos trabajando con el ayuntamiento para establecer un proceso participativo para no solo oírles para escucharles

a una evaluación de sus repercusiones en la red natura dos mil se ha hecho no parece y el primer lugar que se está analizando montes de iturrieta red natura una zona de especial conservación susceptible de convertirse

y además de interés para aves necrófagas o sea la primera idea es plantear poner palas de más de cien metros en una zona de especial conservación y sensible para las aves

pero la estrategia energética dice más dice que el objeto

adaptado al nivel de desarrollo tecnológico actual de acuerdo y llegando a los consensos necesarios para su aprobación efectivamente consensos si algo ha quedado claro en esta legislatura

consenso se busca en el pacto por la energía que propusimos y de pactos de país por la energía ha hablado el lehendakari hablaba todo el mundo para terminar haciendo qué lo de siempre porque yo

se ha acordado consensuado algo con la oposición no con la población de alrededor no con el resto de las instituciones no parece

que es un buen documento y es de bastante consenso y dice lo siguiente para la selección de emplazamientos la red natura dos mil se considera

de exclusión viendo esto preguntamos en juntas de araba se va a permitir que se ponga esto

más claro no puedo ser dijo si le digo que es un emplazamiento que tiene restricciones blanco y en botella y yo le pregunto van a pasar por encima de todo y de todos es más le pregunto quién ha decidido esto ustedes con un cuarenta por ciento de participación en haize indar con un sesenta por ciento ustedes para qué están para buscar consensos

para desbrozar el camino con dinero público y luego vender como con eólicas de euskadi eta amaitu nahi dut

zerbitzuaren kalitatea hobetze aldera la nueva propuesta de pliegos de contratación cuenta con informes satisfactorios tanto de la autoridad vasca de la competencia como de la comisión central de contratación el último de ellos remitido a finales de octubre de dos mil diecinueve a finales del mes de noviembre de dos mil diecinueve

las modificaciones propuestas en los pliegos de contratación del servicio además el departamento ha seguido trabajando en otras líneas de trabajo de cara a flexibilizar el modelo y dotarlo de otras alternativas de gestión que permitiera a las asociaciones de padres y madres la gestión

y que pivota sobre la idea de voluntariedad para desarrollar dicha labor y otras líneas de trabajo adicionales eskerrik asko

es cierto que ustedes los tienen preparados pero no me consta a mí que se haya llegado a ningún acuerdo y que esa información que hayan trasladado sea completa yo le voy a pedir a través de una comparecencia pues que venga a explicar ya sé que no puede explicarnos los detalles de los pliegos pero sí que podrá dar detalles de hacia dónde van esos pliegos encaminados

kanpo dauden proiektuak finkatzeko a mí me gustaría que la respuesta que dé el departamento en el mes que le resta para cumplirse el plazo sea lo ágil que necesita esta cuestión sobre todo en lo que se refiere a los pliegos de condiciones de los comedores lo consensuada que requiere esto para superar antiguos conflictos que como usted

y que no se han resuelto satisfactoriamente y por eso estamos aquí y que además la respuesta sea lo suficientemente firme como para que tenga seguridad jurídica y tenga seguridad económica el sistema que salga de este proceso lo que le quiero decir es que

disuelve el parlamento y pone fin a la legislatura podamos pasar página en la siguiente pero

tuvieron una moción en su contra en octubre de dos mil diecinueve han tenido otra moción sobre esta cuestión y no cabe duda de que si no somos capaces de resolver el problema de los comedores

resurgiendo y piden responsabilidades por el trabajo que no se ha hecho eskerrik asko

a finales de noviembre concretamente el veintiocho de noviembre se trasladaron a los representantes de ehige las modificaciones propuestas en los pliegos de contratación como pueden ser el número de lotes duración posibilidades de modificación contractual requisitos de solvencia y criterios de adjudicación así como

el pliego de prescripción técnica relacionadas con el plan de alimentación saludable y como le he dicho estos pliegos han sido informados positivamente por la autoridad vasca de la competencia y el órgano de contratación por lo tanto yo creo que ese paso ya se ha dado tal y como estaba recogido en la enmienda que usted dice por otro lado el nuevo plan de infraestructuras educativas dos mil diecinueve dos mil veintitrés vigente desde junio de dos mil diecinueve ya incorpora actuaciones encaminadas a dotar de cocinas a centros

entendiendo que ello posibilitará que paulatinamente aquellos centros que

creo que estamos en la misma línea y el acuerdo firmado el pasado mes de diciembre con su grupo parlamentario en el marco de la negociación presupuestaria para el dos mil veinte

operativos ordinarios que de forma permanente y con funciones específicas intervienen en donde se produce una emergencia es lo que conocemos comúnmente con número del ciento doce

coordinadores o había mejor dicho porque hay una propuesta de unificación que se está llevando a cabo por parte de la consejería y de osakidetza pero estos centros coordinadores se crean en el año mil novecientos ochenta y tres y se decide que se cree un centro coordinador en que cada uno de los tres territorios históricos y se ha puesto eso sí por una plataforma telefónica única con tres centros coordinadores

los seis de los ayuntamientos cuando hablamos del servicio de emergencias hablamos de las emergencias de osakidetza de las seis de los ayuntamientos y diputaciones de la ertzaintza de la atención de emergencias y meteorología

la habilitación del recurso adecuado estamos hablando además de situaciones de emergencia de salvar vidas humanas de salvar o no una vida y también hablamos obviamente de coordinación de todos

en la prestación de una atención de emergencias quiero recordar eta gogoratu nahi dut hemen sailburu osasun sailburu andrea

como le decía en uno de los últimos pronunciamientos en esta cámara sobre este asunto se hablaba de que se realizara un informe sobre la situación del servicio de emergencias

finales del dos mil diecinueve este grupo no ha tenido conocimiento de dicho estudio le queremos preguntar expresamente si

las conclusiones de dicho estudio en dicho acuerdo también

se señalaba que había que paralizar cualquier decisión de unificar los centros de emergencia

cosa que parece que no ha sido así porque ustedes han seguido adelante con esa propuesta y hablando ya realmente al asunto aunque todo engloba

lo que conlleva esta interpelación me voy a centrar también en la situación del servicio de asistencia sanitaria urgente en euskadi que es objeto de esta

ha habido problemas de coordinación y sobre todo dificultades también a raíz de determinadas noticias que hemos conocido de habilitar o que llegue realmente al sitio que tiene que llegar para atender una determinada emergencia sanitaria pues un recurso

urgencia extra hospitalaria urgente como son en este caso

ambulancias hay un debate señora consejera que usted yo creo que no lo puede negar a tenor de la información también que aparece en los medios de comunicación si tenemos un servicio

una red adecuada redimensionada de ambulancias y

queremos saber su opinión al respecto quiero decir que para este grupo y usted lo sabe

y sobre todo cuando le pasó el testigo el señor darpón me imagino que se lo contaría que

la mejora de la red de transporte sanitario urgente nosotros en los presupuestos consensuados con el gobierno vasco y pactados con el gobierno vasco introdujimos dos

en el año dos mil diecisiete en el año dos mil dieciocho también otra en la margen izquierda y otra en álava

como usted ya sabe para reforzar el transporte sanitario urgente en álava con la petición concreta haya una ambulancia medicalizada más en el territorio alavés como usted bien sabe y me voy a centrar en este último punto en álava existen dos ambulancias medicalizadas

otras que son que tienen la asistencia con enfermería y claramente a tenor de bueno pues los números que se están poniendo encima de la mesa y

problemas que parece que ha acontecido en las últimas las últimas veces con la atención de estos recursos pues parece ser

las dos ambulancias medicalizadas que existen actualmente en el territorio alavés una está ubicada como

en vitoria y otra en llodio pero hay que decir que la que está ubicada en llodio presta atención también a bizkaia ya sabemos y me lo va a decir usted que la red de transporte sanitario urgente

pero lo que es en álava de disposición continua hay una ambulancia medicalizada mientras en los territorios

un número mucho más bondadoso de ambulancias con cinco soportes

y cinco soportes con cuatro soportes en bizkaia más el de llodio por eso hablaba de cinco en bilbao

urioste y en gipuzkoa tenemos cinco en irún en donostia en elgoibar en tolosa y arrasate pero aparte de que comparativamente pues obviamente hay una diferencia teniendo que la ambulancia de llodio presta su

también tenemos que decirle que el número de ambulancias que podemos tener en el territorio alavés esas dos ambulancias que al final se quedan en una

organización mundial de la salud porque recomienda una unidad por cada

habitantes y por tanto los criterios poblacionales no se cumplen ya le digo que yo ya sé

de la asistencia sanitaria urgente extrahospitalaria y que se trabaja en red

pero poniendo estos números encima de la mesa y nosotros ya le digo que esta cuestión nos ha preocupado y que introdujimos cantidades concretas para mejorar la red de transporte sanitario urgente en los tres territorios creemos que en este momento pues esta cuestión

atendida y que se tienen que redimensionar especialmente

de este servicio y como le decía una cuestión son los recursos específicos para esta atención pero nos preocupa también todo lo que tiene que ver con el servicio de emergencias

con la decisión tomada en su momento de centralizar

creo que la decisión que en su momento se tomó de tener tres servicios centralizados era buena porque cada territorio tiene sus propias características los que atienden

ofrecer una información y un conocimiento de la zona mucho mayor y obviamente si tenemos todo centralizado en bizkaia también como usted sabe recientemente pues ha habido algún problema de que se ha caído el sistema y ha habido que tirar en ese caso

si no recuerdo mal de las infraestructuras de otro territorio por eso creo que todas estas cuestiones tienen que ser aclaradas señora consejera y más cuando este debate es un debate de actualidad y por eso le preguntamos expresamente si es intención de este departamento el departamento que usted dirige mejorar el servicio de asistencia sanitaria urgente con el objeto de dar una atención adecuada a la ciudadanía besterik gabe eskerrik asko

presidente andrea legebiltzarkideok garrido andrea en los últimos días estamos asistiendo a una campaña

sin argumentos e indicadores solventes el servicio de transporte sanitario urgente y de paso crear alarma y asustar a la población en un tema tan sensible da la sensación que se han puesto de acuerdo todos para criticar

de ambulancias de material un mal servicio y ustedes lo que están haciendo en realidad es obviar

y está compuesto por un gran número de profesionales junto a equipamiento y protocolos asistenciales y de coordinación que logran a diario salvar vidas

que los traslados urgentes en ambulancias tanto en araba como en bizkaia o en gipuzkoa no solo están totalmente garantizados sino que se realizan con calidad y de la mano de profesionales cualificados y material y equipamientos de alta calidad vaya por delante mi reconocimiento público al conjunto de los más de mil profesionales

mi reconocimiento y agradecimiento por su buen hacer especialmente a todos aquellos que han estado o están participando en este momento en el incidente que tenemos

se está ofreciendo una asistencia sanitaria urgente adecuada y de calidad al conjunto de vascos y vascas nosotros siempre estamos dispuestos a mejorar pero le puedo garantizar que se está dando una atención adecuada a la ciudadanía lo hemos explicado más de una vez y lo voy a volver a hacer ahora

es decir se distribuyen por todo euskadi y trabajan en red de una manera coordinada como usted ha mostrado que conoce emergencias de osakidetza trabaja con recursos de diferente cualidad

y para ello contamos con ambulancias de soporte vital avanzado con enfermería y con médico

exclusivamente con enfermería ambulancias de soporte vital básico ambulancias no asistenciales

y también con personal facultativo y de enfermería que asisten en el domicilio por todo esto

se constituye lo que es la red asistencial gestionada por los médicos coordinadores que además junto al consejo sanitario prestado por el personal de enfermería ofrecen asistencia mediante el consejo sanitario los trescientos sesenta y cinco días del año las veinticuatro horas del día

y le voy a ofrecer algunos datos orientativos desde que se abre un incidente hasta que se asigna un recurso pasan entre tres y cuatro minutos de media

el incidente y sale una ambulancia la media es de un minuto y cuarenta segundos

tiempos como le digo teniendo en cuenta todo el territorio de euskadi y la diversidad de gravedad con la que son las llamadas catalogadas en el triaje

es cierto se podría mejorar estar en red significa no tener los diferentes tipos de recursos concentrados sino repartidos y con capacidad de actuar en todo el territorio en un intento de proporcionar la ayuda sanitaria inicial a cualquier persona allí donde se encuentre

en el caso de ser necesario es cierto como usted ha señalado trabajamos en red vuelvo a repetirlo ningún recurso es ni debe ser

coordinada el año pasado por ejemplo se consiguieron atender en los tres centros coordinadores de bilbao donostia y gasteiz más de

e incidentes una cifra que demuestra la capacidad de esta red

de la confianza que este servicio genera en la sociedad vasca que acude a ella siempre que lo necesita usted se refiere

en este territorio por ejemplo además de los recursos asignados

en llodio también en amurrio y las dos ambulancias de gasteiz se respalda la cobertura de soporte vital avanzado con una ambulancia de arrasate y con el helicóptero

que en el nuevo concurso de la red de transporte de servicio urgente que estamos a punto de adjudicar hemos ampliado en doce horas la cobertura de una de las ambulancias

básico de vitoria gasteiz por lo que esta va a funcionar las veinticuatro horas del día y como usted ya sabrá esto supone bastante más que duplicar su coste por tanto solo en vitoria gasteiz en dos meses

una ambulancia de soporte vital avanzado con médico veinticuatro horas una ambulancia de soporte vital avanzado con enfermería veinticuatro horas tres ambulancias de soporte vital básico las veinticuatro horas

doce horas además de esta red de transporte sanitario de urgencias a la que me acabo de referir araba dispone también de la red de personal sanitario una red compuesta por médicos y enfermeras de atención domiciliaria que ofrecen asistencia sanitaria tanto a nivel rural

se realiza teniendo en cuenta a todos y todas ellas y ellos y su capacidad asistencial tanto individual como en actuaciones en equipo también añadiré que todos los recursos de emergencias de osakidetza están distribuidos en euskadi en base

pero también teniendo en cuenta otros factores que están establecidos y el número de asistencias que anualmente reciben y realizan en euskadi tenemos distribuidas sesenta y nueve ambulancias básicas

once de soporte vital avanzado con enfermería y médico y además el helicóptero que cuenta con una dotación de materiales equiparable a un soporte vital avanzado

disminuir los tiempos de respuesta en el transporte de pacientes críticos entre hospitales mejorando la red de seguridad del paciente etcétera además la dotación de personal de emergencias de osakidetza

así en el año dos mil quince la plantilla la formaban doscientos cuarenta y cuatro trabajadores y hoy en día la componen doscientos setenta y siete profesionales este aumento de personal quiere decir que la apuesta por parte del departamento de salud

respecto a emergencias es firme y clara y damos pruebas de ello

es el esfuerzo que el año pasado se realizó por ejemplo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de emergencias así el diez de abril del pasado año la dirección general de osakidetza

alcanzaron un acuerdo un acuerdo que supuso el reconocimiento de determinados complementos de carácter específico que venían las condiciones particulares de los puestos de trabajo de emergencias así como el solape horario para todo el personal de dicha organización asimismo proceder a la apertura de bolsas de contratación para el personal conductor de emergencias también es significativo y seguro que usted es muy consciente de ello el compromiso por el empleo de calidad que tiene este gobierno y muestra de este compromiso de empleo de calidad del gobierno se demuestra

el impacto de las mejoras en el nuevo convenio colectivo autonómico del sector que ha entrado en vigor el uno de enero es decir señora garrido estamos dando pasos continuamente para mejorar y dar el servicio de calidad que todos queremos dar orokorrean

por la información obviamente muchas de las cosas que usted ha dicho aquí ya las conocíamos pero yo creo que usted se tiene que preguntar claramente

que está viendo por parte de todos en relación con el transporte sanitario urgente porqué hay tantas noticias es decir yo para nada cuestiono un servicio de calidad

para hacerlo pero sí que critico la forma de gestionar y cómo se coordina este servicio y también por eso le he preguntado si usted cree

la red de transporte sanitario urgente en nuestra comunidad autónoma hombre no me diga que claro es que se habla de esto efectivamente porque usted sabe que al final del año la ute que gestionaba este servicio decidió no seguir con el contrato y hubo que buscar

de urgencia que hemos visto todos circulando con no los colores precisamente a los que estábamos acostumbrados por lo tanto

y por lo tanto yo creo que eso ha sido obviamente recogido en los medios de comunicación por otra parte usted también sabe las reivindicaciones por parte

que obviamente también tiene sus razones sobre también las cuestiones que se plantean en relación a la forma en que se organiza un recurso que como le digo es esencial y hay problemas también de coordinación no me ha dicho nada en relación a la centralización del servicio de emergencias en vizcaya no me ha dicho absolutamente nada yo le he preguntado expresamente por un acuerdo en esta cámara

de emergencias y no me ha dicho nada de este estudio entiendo que no está realizado

las conclusiones de dicho estudio no nos ha dicho nada en relación a la decisión también

los problemas que hubo con la caída también del sistema

y nos ha dicho en relación a esta decisión cómo están las cosas por lo tanto creo que nosotros señora consejera lo que hemos hecho es traer a esta tribuna cuestiones que están en la calle y cuestiones de las que se hacen eco los medios de comunicación

del tema cómo funciona la red sanitaria de transporte urgente en nuestra comunidad autónoma

pues por la proximidad trabaja más en el territorio

que la de arrasate en algunas ocasiones no siempre cuando se le puede demandar puede venir

muchas veces está ocupada y también sabemos que está el helicóptero pero mire la preocupación de este grupo por este tema ha sido

y tan prioritaria por decirlo de alguna forma que esas mejoras de las que habla usted en la red de transporte sanitario urgente tanto en los tres territorios ha venido

de la mano del partido popular y quiero recordarle señora consejera que en el año dos mil diecisiete se introdujo una partida concreta para mejorar la red de transporte sanitario tanto

y en el año dos mil dieciocho en la margen izquierda en álava y le voy a recordar también todo el episodio en relación

de bidasoa por lo tanto desde este grupo lo que le pedimos

nos remita ese estudio para conocer la situación del servicio de emergencias cómo están los recursos que si hay que redimensionarlos o no pero está claro que el sistema tiene deficiencias señora consejera no se cuestiona la calidad de un servicio pero el sistema tiene deficiencias y más cuando últimamente ha habido acontecimientos se ha pedido ambulancias las ambulancias no han llegado y ha tenido que hacerse ese transporte

en lugares del territorio histórico de álava en el conjunto de la comunidad autónoma del país vasco muchas veces hay problemas para que llegue una ambulancia

al servicio de urgencias correspondiente por lo tanto lo que le pedimos
es saber si usted va a introducir mejoras y subsanar las deficiencias que están detectadas hasta el momento besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea murga andrea zurea da hitza

me alegro que no cuestione la calidad del servicio que prestan los servicios

ocasiones puntuales creo que es injusto que dude de la coordinación y de la gestión que se realiza lo vuelvo a remarcar trabajar en red significa no tener los diferentes tipos de recursos concentrados

que acuda a un pueblo próximo acuda y que esto lo coordine un centro y unas personas con unas directrices y protocolos técnicos medimos los tiempos medimos las necesidades y actuamos con criterios para dotar las zonas y coordinar y ver dónde son necesarios los recursos nadie sabe dónde ni cuándo va a ocurrir una emergencia la labor de emergencias osakidetza consiste en la gestión planificada de la incertidumbre

por eso tenemos distribuido al personal formado y preparado de emergencias y todos nuestros recursos en todas las zonas de euskadi para poder llegar allí donde sea necesario un transporte y una atención sanitaria urgente

y con el apoyo de distintos recursos cercanos que existen en el marco de esa formación continuada del personal de emergencias creo que es importante destacar el convenio que recientemente también ha firmado emergencias de

con arkaute un convenio de formación que permitirá a profesionales de la ertzaintza bomberos y policías locales

para actuar en casos de emergencia y que va a ser impartida por profesionales sanitarios será la primera vez y estoy segura que va a constituir un paso importante nuestra labor ya sabe que consiste también en la planificación de los recursos no nos negamos a seguir analizando las necesidades

procedemos a revisar las zonas con mayor demanda de forma habitual y los tiempos de respuesta para introducir cuando hace falta recursos adicionales y el estudio que me solicita está en marcha como se dijo y se entregará según

ya he señalado que acabamos de reforzar la atención en vitoria gasteiz ampliando en doce horas la cobertura de una de las ambulancias de soporte vital básico usted se ha referido en su intervención también a la situación que se vivió a finales de diciembre

sin embargo ni se le ha pasado por la imaginación poner en valor el importante esfuerzo que se realizó desde el departamento de salud para solventar esta situación

ante la negativa de la empresa a continuar con el contrato el departamento de salud fue capaz de garantizar que a partir del treinta y uno de diciembre a las doce horas de la noche el servicio necesario para la ciudadanía tuviera respuesta a sus necesidades asistenciales similar y de calidad aspectos asistenciales de calidad por eso

se está ofreciendo una asistencia sanitaria urgente adecuada al conjunto de vascos y vascas eta hemendik aurrera ere

consejeras compañera murga compañeros y compañeras parlamentarias vivimos tiempos nuevos no me refiero a la

al barcelona o de la real al real madrid que son tiempos nuevos

al blindaje de los derechos sociales no solamente los presupuestos del gobierno vasco sino

el blindaje de los derechos sociales su fortalecimiento su profundización y su extensión

la línea fundamental al menos de nuestro grupo de desarrollar de hecho el blindaje del sistema nacional de salud y del derecho a la salud

que se han firmado en el acuerdo del nuevo gobierno yo voy a intentar muy breve dar unas pinceladas a algunos temas de actualidad de nuestro sistema público de salud

privado de salud en euskadi y unas cuantas propuestas para acabar planteando a la compañera murga si no está

establecida una política de evaluación de chequeo de revisión de nuestro sistema de colaboración público privada

sistema público tiene que ver con los derechos sociales de la gente y el gobierno tiene que ver con la gestión de los derechos de forma equitativa para todos en salud y el actor privado tiene que ver con el negocio yiene que ver con los beneficios

osakidetza doce mil médicos

once hospitales de agudos más del setenta por ciento del total de las camas de euskadi

hemos pasado de veintiséis mil y pico a veintisiete mil y pico de modo que las plazas estructurales se amplían y las plazas funcionales que llegan hasta treinta y cinco mil disminuyen

asimismo vayan aumentando el porcentaje de fijeza de nuestra plantilla siempre un problema

más de quince centros de salud en nueva construcción más de ciento cuarenta plazas de nueva creación en atención primaria no me refiero a las últimas de dirección general de osakidetza de veintitantas plazas de pediatría y noventa

a vacantes que se van a cubrir a resultas de la última ope yo me refiero a plazas

la atención primaria y su capacidad de resolución de los problemas

una actitud por parte del gobierno de revisión de las políticas de acceso a las ofertas públicas de empleo

etcétera etcétera tenemos un par de problemas en osakidetza mantenemos cerca del treinta y dos por ciento de precariedad de la plantilla

y tenemos algún problema con mejorar las coberturas del sistema no solamente en la atención a emergencias

para las emergencias y los accidentes si tenemos tan buen personal en emergencias en osakidetza

con la calidad profesional que tiene nuestra plantilla bueno hay que mejorar las coberturas no solamente en soporte básico vital que se comentó antes sino en la salud bucodental

en los nuevos presupuestos bueno vamos de una manera o de otra fortaleciendo el sistema público de salud

pero no me refiero solamente a eso me refiero a la colaboración público privada que es por lo que he salido a hacer esta interpelación

bueno de un sector que ocupa más del treinta y tres por ciento del total de la prestación sanitaria

veintiuno por ciento del total de la actividad de intervenciones quirúrgicas del total de la comunidad autónoma

en el imq en el dos mil dieciséis había

con un incremento exponencial a partir de la crisis

el sector privado aumentó la inversión el dieciséis por ciento y el sector público

la inversión el once por ciento dos mil

son datos del sector privado no son datos ni siquiera míos y es lógico que pase esto siempre que aumentan las

aseguramiento privado siempre que aumenta la cobertura de la gente que por cierto

a sesenta años no los mayores de setenta años que son siete veces menos que los de veinticinco a sesenta años me entendéis lo que quiero decir verdad no es la gente más frágil la gente mayor

esto se llama selección adversa de riesgos lo rentable y lo fácil al sector privado

estancia pequeña una apendicitis a una persona joven los pacientes de riesgo

mayores y los más frágiles

hay cuatro formas de caracterizar más o menos

cuatro maneras una que no se suele tener en cuenta es

tú estás diciendo lo de los conciertos no no me estoy refiriendo a los conciertos

en medicamentos en el fisio en el otro en la póliza del seguro

dkv veintiseis coma ocho por ciento del gasto sanitario total no del presupuesto de osakidetza del gasto sanitario total externalizaciones se pararon

gracias al tribunal contencioso administrativo hay que revisarlas ciento cincuenta y cinco millónes en presupuestos dos mil veinte conciertos oye uria que tenemos los conciertos más bajos de todo el estado escasamente el seis por ciento

a doscientos veinte millónes es cierto hay que revisarlos ambulancias

y consultorías consultorías privadas para todo la última que me acuerdo

a una consultoría para que le prepare las bases de las estrategias de los para una nueva ley de salud pública que todavía no ha salido señora consejera una nueva ley de salud pública

está en irekia para el que quiera consultarlo consultorías

bioef tenemos buenos epidemiólogos y epidemiólogas por qué tanta consultoría privada así pues

externalizaciones conciertos y consultorías o asesorías ese es el sector privado

ahí se nos van unas cuentas pesetas qué proponemos muy sencillo

y revisar como están haciendo en el resto del estado y se va a extender más el conjunto de conciertos y externalizaciones en términos económicos y de impacto en salud

en el marco de la equidad no es el mercado el mecanismo más eficiente de asignación de recursos

los sistemas públicos de salud no es el objetivo abrir todo tipo de espacios a los servicios privados ampliando tanto como sea posible las oportunidades de nicho de negocio los jefes de servicios de osakidetza no pueden ser

no importa es un tema fundamentalmente de competencia desleal

para que vayan también al sector privado a ayudar al jefe

incompatibilidad en los jefes de servicio de osakidetza sector público sector privado

presidente andrea legebiltzarkideok uria jauna usted y yo compartimos y defendemos que osakidetza es un logro del conjunto de la sociedad vasca

entre todas y todos un sistema sanitario público universal y de calidad y resalto su frase de que el sistema sanitario vasco

con las actuaciones que está realizando en relación a inversiones recursos humanos y otras y se lo agradezco sin duda tenemos en nuestro sistema cosas que mejorar y a ello nos dedicamos a diario

ya sé que no debemos tener algunos de ellos como referencia podemos sentirnos orgullosos de ver que provocamos una sana pero nunca mejor dicho envidia en nuestro entorno tanto en términos de financiación pública como en términos de resultados actividad calidad y resultados en salud un par de ejemplos hace más de una década que euskadi está a la cabeza del gasto sanitario público por persona utilizando la estadística oficial del ministerio de sanidad y las del instituto nacional de estadística en el último año de la serie histórica desde dos mil diecisiete euskadi

per cápita mejor dicho ha invertido cuando la media del estado se quedaba

es decir un veinticuatro por ciento por encima de la media la apuesta del gobierno vasco por osakidetza ha sido continuada

y muestra de ello es que euskadi este año también sigue estando a la cabeza del estado en gasto per cápita y este año dos mil veinte destinamos

por persona por lo tanto comparto con usted señor uria que como reconoce en la justificación de esta interpelación

está por encima de la mayor parte de nuestro entorno bat etortzen gara eta eman ditudan datuak argiak dira eta

en múltiples y continuados rankings de servicios de salud de las comunidades autónomas encabezamos las primeras posiciones en la calidad del servicio en los últimos tres años

que también conoce como yo euskadi ocupa de manera alternativa con navarra las dos primeras posiciones como mejores servicios sanitarios del estado

hace referencia al porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados en esos informes se puede apreciar que euskadi no destaca para nada es más

euskadi está situada en un lugar intermedio lo que significa que las partidas que se dedican a concertar determinados servicios son algo normal

de sistemas sanitarios públicos usted además también es consciente de que las aportaciones económicas en conciertos en euskadi en los últimos años

este año dos mil veinte el departamento de salud dedicará a conciertos como usted ya ha mencionado menos de un seis por ciento de su presupuesto una cifra reducida y en términos de porcentaje como le decía en la media de lo que dedican los servicios de salud del resto de comunidades autónomas o me atrevería decir que incluso está por debajo entre dos mil doce

el gasto en conciertos ha pasado del siete coma dos por ciento al cinco coma noventa y siete por ciento de todas formas señor uria le diré

que puede ser natural y necesaria y que no siempre hay que mirarla con recelo además creo que habría que recordar en esta cámara que los principales servicios concertados que tiene el departamento de salud son los hospitales psiquiátricos de media y larga estancia en gipuzkoa san juan de dios aita menni la fundación matia la clínica de la asunción en tolosaldea la red de transporte sanitario programado y urgente la oxigenoterapia y otras terapias respiratorias domiciliarias y algunas intervenciones quirúrgicas y pruebas complementarias que se utilizan para mantener

también no debemos olvidar que las empresas especializadas que prestan estos servicios también generan empleo y riqueza pagan sus impuestos y es la administración pública quien a través del cumplimiento de la legislación vela por la libre concurrencia en los concursos y por la calidad

servicio que prestan lo cierto es que el debate público privado la referencia clave es la de la titularidad pública o privada de los fondos que se ponen en juego todo lo demás aun siendo importante

bastante circunstancial y por supuesto que para realizar esto revisamos con criterios de equidad creo que es un error conceptual mezclar sin más el gasto de los hogares con la externalización de algunos servicios generales o confundir

atender a que la cobertura prestacional y económica de esta última corre a cargo de los fondos públicos

puede depender tanto de la cobertura de prestaciones como de la disponibilidad económica de las familias de los precios o de tendencias sociológicas y no cabe diagnóstico acertado alguno si no se hace una disección minuciosa de cada detalle y al mismo tiempo aunque parezca paradójico

el aseguramiento sanitario público vasco y su consiguiente financiación cubre todas las prestaciones reconocidas en el ámbito del sistema nacional de salud e incluso cubre algunas más y todas ellas con un nivel de calidad razonablemente elevado

es como usted ha mencionado que aquellos pacientes con patologías más complejas o pacientes crónicos o polimedicados en quien confían

eta euskal gizartea harro sentitzen da a partir de ahí que algunos servicios no se financien gafas o cirugía estética no es lo mismo o que los ciudadanos por los motivos que sean prefieran suscribir un seguro privado es otro debate que nada tiene que ver con

que tenemos como administración sanitaria de cubrir adecuadamente los servicios seguir consiguiendo que aquellas personas que realmente necesitan

la tengan y la tengan de calidad y el que opte a aquellas como usted ha mencionado puedan elegir pues sean libres

ese veintiséis coma ocho por ciento y otras cifras a las que usted ha hecho referencia en sí creo que significan muy poco sobre la calidad

hubiera preferido que nos pudiéramos centrar en un debate sobre la cuestión del copago por ejemplo que es un componente relevante de dicho gasto privado y sobre el que como usted bien sabe en estos años hemos acometido todo el margen de maniobra que teníamos

la propia existencia de servicios privados y que algunos ciudadanos opten por una doble cobertura es una opción legítima que respetamos por nuestra parte de lo que debemos preocuparnos es de dar la mejor respuesta posible en términos de salud poblacional sin demonizar a nadie y

el esfuerzo financiero que hacemos y los resultados que se obtienen están claros y creemos que están en armonía con las aspiraciones de la gran mayoría de la población vasca por lo tanto en base a los resultados globales que le he dicho exponiendo

que no tengo clara la pregunta se refería a una auditoría el sentido de la auditoría que usted propone eskerrik asko

compañera murga la pregunta es muy sencilla no

es urgente si tenemos más de cuatrocientos millónes

que va al sector privado revisar la calidad de la prestación en términos de eficiencia y en términos de impacto en salud esa es la pregunta y qué es el sector privado a dónde llegan los cuatrocientos millónes de euros de osakidetza

llegan a consultorías y llegan a conciertos usted ha dicho la verdad los conciertos vamos para abajo es verdad y con la vinculación del oncológico a osakidetza más para abajo todavía efectivamente no llegamos ni al seis por ciento

si la fuente de conflictos permanente en externalizaciones por ejemplo en el tema de las ambulancias o en otro tipo de conciertos o consultorías tenemos

de investigación e innovación nuestros cerebros cincuenta y dos por ciento de la plantilla están en precariedad o en hay gente que lleva catorce años que tiene

de ochenta y dos plazas de plantilla qué quiero decir como no revisemos cada euro que va al sector privado con los mismos indicadores de calidad que utilizamos para el sector público los del contrato programa con los mismos indicadores de eficiencia que utilizamos para nuestros propios servicios con los mismos indicadores de calidad en la atención que utilizamos en nuestros propios servicios yo creo que no estamos haciendo

del sector privado de forma exponencial además en los últimos años

es porque se han disparado las listas de espera y teniéndolas las más bajas del estado

de urduliz como usted muy bien sabe la gente se

una póliza por cierto que ya se encargan los seguros privados de tener cada vez menos prestaciones

va al sector privado y se gasta su dinero en las pólizas porque tiene algunos problemas en la calidad de la prestación y en las coberturas de prestación del sistema público o aquí el estudio lo avala uno de los indicadores mayores son las listas de espera pero no solamente

humildemente es que cuanto antes es muy conveniente que tengamos criterios de evaluación del conjunto de conciertos y externalizaciones que osakidetza realiza

yo no estoy en contra de la privada estoy a favor de lo público que no es lo mismo el otro día

pescadería de cabecera que está en el mercado municipal de deusto dos mujeres tendían la siguiente conversación esto lo he contado varias veces pero a usted no dice oye oye miren que te has hecho del igualatorio y dice sí me he hecho sí

y no tengo mucha lista de espera ya sabes bueno para los problemas urgentes en osakidetza cada vez tienen menos lista de espera para los problemas urgentes bueno pero no ha sido solo por eso es también porque

más grave pueda estar en una habitación por ejemplo aquí mismo en basurto

es que son los mismos médicos los de basurto y los del igualatorio sí pues precisamente porque son los mismos médicos por qué te sales de

el igualatorio esto es una caricatura de la realidad

como no tengamos una actitud proactiva de blindar

de establecer las incompatibilidades en los jefes de servicio y corresponsabilidades de gestión clínica de mejorar las coberturas del conjunto del sistema

de acuerdo en que no estamos por la privatización del sistema público de salud ni lo hemos estado nunca el departamento ni lo vamos a estar y

concretos que lo demuestran y me voy a referir a la conclusión de un reconocido profesor que es un experto en sistemas sanitarios que es el

que usted conoce y le lee este profesor concluía en uno de sus artículos en los que evaluaba en qué servicios aporta más o menos un concierto y concluía que el balance de ventajas e inconvenientes potenciales y en nuestro contexto parece ser positivo

en servicios generales muy dudosa la concertación en los servicios centrales y poco recomendable en servicios y centros clínicos

se corresponde con estos servicios generales en los que ya le digo los propios expertos en estas áreas concluyen que el riesgo

es menor además este profesor también considera que una de las debilidades mayores de la externalización

entre comprador público y proveedor externalizado lo que lleva a que la eficiencia y la calidad estén en riesgo si no se mejoran o modulan los modelos de contratación y los indicadores de desempeño en este sentido

el departamento de salud en sus contratos ya establece mecanismos de control como es el contrato programa y por ejemplo en el concierto de las ambulancias la coordinación y su actividad

desde emergencias y se mide acorde a los mismos criterios cualquiera de las ambulancias que acuda y el servicio que dé zuk ondo dakizu

aportarle más datos y ser más transparente todavía le diré

es en un treinta y dos por ciento dedicada a transporte sanitario

a conciertos ambulatorios en un veintisiete por ciento a actividad quirúrgica en un trece por ciento a salud mental y en un once por ciento

por lo tanto quiero volver a repetir que no tengo claro la utilidad de esas auditorías sino mejorar esta forma de evaluación

externalización de servicios con acción concertada porque son dos aspectos

agentes motivaciones y procedimientos completamente diferentes tampoco considero adecuado hablar de conciertos genéricamente y aplicar a todos ellos

de eficiencia porque cada uno responde a motivos y a circunstancias distintas en conclusión y dicho de otra manera no tenemos intención de acometer una auditoría que usted propone a seguir con el control riguroso en la adjudicación y evaluación de estos servicios pero siempre hemos estado y estaremos la factibilidad y el rigor metodológico de su propuesta y por supuesto a actuar en consecuencia y le invito a que aporte ese conjunto

coincido con usted señora ubera en que como señala en su pregunta las emergencias son un eslabón fundamental de los servicios sanitarios y no pueden fallar de ahí

y hoy especialmente a las personas que están en zaldibar y a este trabajo que realizan un conjunto de profesionales

la capacidad de gestión del departamento de salud incluso ante imprevistos porque puedo entender que tengan día sí y día también

al sistema sanitario pero también entenderán que nuestro trabajo es

en el que a diario confían la salud miles de vascos y vascas

seguimos ampliando el presupuesto para mantener y reforzar en euskadi un sistema público y de calidad y también en emergencias mientras que

a la renuncia de una de las empresas adjudicatarias a seguir prestando el servicio yo quiero destacar

margen de tiempo y en unas fechas realmente complicadas realizó la situación y la resolvió actuamos de manera rápida

como así fue que ninguna persona que tuviera que ser trasladada en ambulancia con urgencia con posterioridad a las doce de la noche del treinta y uno de diciembre careciera de este servicio y se garantizó que este fuera de calidad gabon zahar egunean

señora ubera vuelvo de nuevo a invitarle a que mire los presupuestos del departamento para el dos mil veinte

dentro de los conciertos ha aumentado un catorce por ciento respecto al ejercicio anterior esto se debe a que hemos asumido el coste que supone la aplicación del convenio colectivo autonómico del transporte de personas que tantas veces ustedes nos urgieron a favorecer y que por fin es una realidad

uno de enero siempre se mira o se señala el vaso medio vacío eso equiparará las condiciones de todos los trabajadores del sector y las mejorará sustancialmente pero eso está claro que no interesa ponerlo en valor en este momento

a este respecto y que le pidiera su valoración sobre el papel que ha jugado el departamento de salud en la consecución de este acuerdo le vuelvo a recordar

volverá a ser este año la comunidad autónoma que más dinero a la salud y por lo tanto no me gusta que se hable continuamente de privatizaciones del sistema el servicio de ambulancias en euskadi

comunidades autónomas es un servicio externalizado

muchísimos años y todavía está por demostrar que sea menos eficiente que gestionarlo exclusivamente con recursos públicos un servicio que no hay que olvidar

de mayor calidad y que desde el departamento de salud se regula y contrata en base a unos concursos públicos y a unas normas concretas de calidad que deben respetarse

efectivamente a la oposición nos toca hacer control y crítica al gobierno eso es lo que plantean en la ley pero también hacemos propuestas

por ejemplo este tema de la pregunta de hoy que le voy a hacer es una iniciativa que propusimos en la comisión de salud que le pareció muy interesante

que es montar unidades de rehabilitación en centros de salud de atención primaria para patologías complejas efectivamente no solamente le pareció bien sino que montó

en el centro de salud de zaramaga en gasteiz se ha hecho una evaluación más de quinientos pacientes han aparecido por el centro es un éxito y se ha decidido

la experiencia extender la experiencia que en los presupuestos que hemos apoyado pues hablamos de un número de fisioterapeutas para poder

montar varios centros de rehabilitación en los centros de salud de atención primaria

a personas mayores se desarrollará algún centro de estos porque claro ya me han comentado que se está extendiendo ya en vitoria se desarrollará algún centro de estos que es por lo que he salido aquí por mi preocupación en la margen izquierda

presidente andrea legebiltzarkideok uria jauna el proyecto del despliegue de la fisioterapia como parte de la cartera de servicios de atención primaria

en nuestra estrategia de atención primaria de euskadi para el conjunto de euskadi por supuesto también en el área en la que usted se refiere y estamos convencidos de que va a proporcionarnos resultados muy positivos y por ello

pero de forma progresiva al conjunto de unidades de atención primaria de todo euskadi el primer pilotaje de esta acción

el objetivo facilitar la derivación de pacientes desde atención primaria a fisioterapia bajo un protocolo de tratamiento consensuado con el servicio de rehabilitación como sabrán

para contribuir así al empoderamiento de pacientes además propone trabajar en coordinación con el programa de actividades deportivas municipales para así mejorar

les diré que en este momento son casi setecientos pacientes los que se han beneficiado de este programa derivados de cinco unidades de atención primaria zabalgana sansomendi san martín en una primera fase

en una segunda añadiré que los resultados del pilotaje que hemos llevado a cabo son satisfactorios y que a fecha de veintitrés de enero de este año la población potencial sobre la que el programa está disponible

al mes en más de un sesenta por ciento de los casos prácticamente la totalidad

y la mejoría clínica es de un ochenta y cinco por ciento de los pacientes evaluados con un grado de satisfacción cercano a nueve sobre diez

veintidós exactamente puedan derivar pacientes por ello

concretamente para el quince de marzo habremos habilitado dos nuevos gimnasios en salburua y lakuabizkarra beraz uria jauna

eta gipuzkoara para realizar este programa

aspectos estructurales y también de adecuación de plantilla y el realizar un pilotaje progresivo evaluando creemos que es la fórmula de hacerlo
y por supuesto que tenemos previsto llegar a toda euskadi eskerrik asko eskerrik asko murga andrea

mi pregunta era porque digo si se extiende a más unidades de rehabilitación a más centros de salud en gasteiz estas unidades de rehabilitación que tienen éxito

nos quedamos sin plazas me dije yo nos quedamos sin plazas de fisioterapeutas entonces digo yo vamos a ver vamos a

el tema de las desigualdades de salud el tema del criterio de necesidad en la punta de nuestras decisiones

mayores de sesenta y cinco años los más mayores de todo euskadi

con pasaia y con basauri las tasas de paro no diez por ciento las más altas

las listas de espera en rehabilitación que las he visto la semana pasada las más altas junto con bilbao

pero claro si ustedes ponen tres o cuatro centros de rehabilitación

con fisios dos por cada uno me he puesto a calcular y digo no les llegan o sea no va a haber

en aquellos colectivos más vulnerables que en mi opinión son margen izquierda pasaia y basauri pues hasta dentro de cuatro años

y sabe que esta apuesta es firme y que además creemos en la atención primaria

quienes han puesto esta actividad y la están impulsando

en estos últimos años a partir de la estrategia de atención primaria por ello como ya le he señalado nuestros esfuerzos durante este semestre se van a centrar

la fisioterapia en el territorio alavés y posteriormente

vamos según los recursos que como usted ya ha mencionado son necesarios a realizar su extensión en la medida de estos recursos

también contando con la reorganización priorizando su extensión como siempre en virtud de las necesidades detectadas y de la estructura física existente

teniendo en cuenta las desigualdades de salud eskerrik asko eskerrik asko

que tenía un título muy curioso decía el título no sé si casarme o comprarme un perro y yo me encuentro casi en un dilema existencial

realmente no sé si hacerle a usted una interpelación sobre los futuros planes de su gobierno o pasar directamente ya la fase de exaltación de la amistad despedirme de algunos que no estaremos o no estará no se sabe quién estará y bueno pues pedir perdón a los ofendidos y perdonar a los ofensores e irnos al final todos

de rioja por supuesto lo llamen como lo llamen y esperemos que se llame como se debe llamar

situación un poco paradójica esta puede ser la última intervención del último pleno de esta legislatura

en un sainete parece ser que el departamento de comunicación de urkullu está muy interesado en encontrar la forma de echarle la culpa a los demás

voy a cobrar igual y voy a trabajar igual y voy a tener que hacer la interpelación igual pero me parece un poco triste que la sociedad esté así porque hay gente que está mirando a las cosas que se están tramitando aquí

cómo van a quedar y yo creo que teníamos que tener un poquitín más de claridad no pero en esta situación paradójica ekin diezaiogun gaurko gaiari eta gaurko gaia esaten nuen moduan bazen

bi tanta bi lagin adibideen ozeano batean lehenengoa prentsaren titular bat cierran tres comercios históricos de la parte vieja

el reconocimiento a un sector fundamental para nuestra sociedad el sector del comercio como hemos comentado en más de una ocasión sufrió los efectos de la crisis con una mayor intensidad que otras áreas de la actividad económica y ahora se enfrenta a una reconversión que está motivada fundamentalmente por los cambios sociales en el consumo el comercio vasco está asentándose con un modelo más competitivo mejor preparado y más profesionalizado los datos que ofrece en el último índice de comercio minorista como usted ha señalado las ventas del sector minorista en la comunidad autónoma han subido un dos coma uno en el tercer trimestre y efectivamente el acumulado del año ha sido un cero coma nueve

y aun habiendo descendido el número de establecimientos en un dos coma nueve por ciento

un cambio de modelo que se está dando de manera paulatina que tiene el acompañamiento de las instituciones en forma de programas de formación emprendimiento

hemos realizado una apuesta por el pequeño comercio por una ciudad con identidad comercial propia y diferenciada así como por el desarrollo comercial de los barrios más desfavorecidos en el texto de su interpelación usted aludía a las acciones que hemos adoptado tras el pleno monográfico en ese sentido quiero destacar que muchas de las acciones

en base al plan estratégico de comercio dos mil diecisiete dos mil veinte también es cierto que incorporamos muchas recomendaciones muy interesantes y novedosas

y voy a pasar a repasar alguno de los aspectos y novedades más relevantes para dar respuesta a sus preguntas

en áreas como las correspondientes a las campañas de puesta en valor del comercio y comunicación el ejercicio dos mil veinte contará con dos campañas de imagen del sector comercial minorista

del comercio y prestigiarlo profesionalmente en cualquier caso seguimos apelando a este parlamento para que continúen con el compromiso que asumieron todos los grupos en el pleno monográfico

en cuanto a la gobernanza existe un claro compromiso en reforzar las políticas comerciales desde el fortalecimiento del liderazgo público como una forma de trabajo manteniendo una interlocución constante y fluida con el sector con todos sus agentes en concreto con los instrumentos

y también con nuevas figuras en el último año se ha incorporado a los agentes del sector a comisiones y grupos de trabajo de los diferentes proyectos puestos en marcha asimismo también hemos establecido unos foros de reflexión

hemos potenciado la capacidad de las federaciones del comercio vasco

las subvenciones destinadas a sus gastos de estructura y por otra parte estamos elaborando un estudio para obtener una radiografía del sector asociativo comercial en euskadi su dimensión su capacidad de representación y gobernanza para establecer las pautas de las próximas asignaciones presupuestarias y también la modificación del decreto

creemos que la gobernanza y la transparencia deben ser el eje de todas nuestras acciones por eso el departamento de comercio ha incorporado también la evaluación externa

para garantizar la optimización y dinamización de los programas y líneas de ayudas las conclusiones que arrojan estas evaluaciones ya se están incorporando

si hablamos de modernización destacar el programa de apoyo a la modernización de establecimientos comerciales que también refuerzan en este ejercicio la competitividad del sector con ayudas

y a la actualización de equipamientos este programa ha experimentado un profundo cambio en el que se han reformulado sus objetivos estratégicos

bueno se ha sostenido y mejorado el nivel medio de las inversiones y en esta convocatoria en dos mil veinte lo que buscamos es el fomento de proyectos innovadores e inversiones más transformadoras

un éxito de acogida por las empresas en el dos mil diecinueve y un escenario de transformación

con otros programas como hirigune y con la puesta en valor del comercio a los servicios de desarrollo económico municipal por su parte berriz enpresa que es un servicio también que se va consolidando y que facilita la continuidad de los negocios

hirigune sigue siendo el programa consolidado para la hibridación del comercio y economía urbana

en esta convocatoria ampliaremos la formación a los actores implicados y promoveremos las baremaciones a aquellas intervenciones más innovadoras y con mayor capacidad de cambio seguiremos contando con las plataformas urbanas de las capitales como espacios pioneros de innovación nos ponemos como modelo el caso de estudio y de buena práctica vitoria gasteiz para extender la convergencia de políticas de dinamización

una de las acciones aprobadas en el pleno monográfico solicitaba al gobierno o solicitado al gobierno fue la de un esfuerzo suplementario en las denominaciones zonas favorecidas

este año además será el despliegue definitivo del programa denominado turismo de compra responsable que integra el concepto de turismo de compras clásico con la idea de gestión responsable del destino turístico con el fin de integrar el comercio de proximidad y singular

mostrar al visitante una imagen de país singular y sostenible hemos firmado en la reciente edición de fitur

precisamente de entendimiento con el objetivo de profundizar la colaboración y alcanzar metas comunes

el modelo para otros países y regiones gracias al pilotaje de euskadi con la organización mundial del turismo

que la hemos puesto en marcha en este último trimestre del dos mil diecinueve el programa de formación integral del sector del comercio con el fin de vertebrar una oferta formativa referente para la profesionalización y mejora de la competitividad del sector

del sector comercial vasco con contenidos constantemente actualizados planteada con formatos y horarios flexibles y basadas en un asesoramiento personalizado

con la colaboración de diversos agentes del sector se identificarán las necesidades formativas de cara al dos mil veinte esta escuela de todas formas ya ofrece formación online a medida y y supone un soporte transversal del proceso de reconversión y modernización competitiva en el apartado de inteligencia

que incorporará además de las estadísticas oficiales sobre consumo

documentos con tendencias herramientas de visualización y gráficas comparativas dinámicas así como estudios que analizan la realidad del sector y ofrecen consejos de cara al futuro

en el último año hemos dado un salto relevante con un crecimiento del doscientos cuarenta por ciento y en el dos mil veinte dado los buenos

trataremos de aproximarnos una estrategia integrada de digitalización que implica la coordinación con otros programas y la optimización de colaboración con los diferentes agentes del sector espero haber dado respuesta a parte de sus preguntas y si no en el segundo turno seguiré

gracias presidente casanova jauna sí efectivamente en cuanto al modelo de tienda tradicional la figura de tienda tradicional y singular y el apoyo o promoción del producto

ambos conceptos están trabajando dentro del proyecto más global de turismo de compra responsable dentro de ese proyecto como digo lo vamos a desplegar definitivamente a largo de dos mil veinte tiene varias fases de trabajo concretamente tres

la oferta vamos a decir trabajar el mapa de lo que es la oferta qué es lo que tenemos

comercio efectivamente singular con tradición cultural entonces bueno para ver cuáles son todos aquellos posibles agentes

ambos conceptos los vamos a trabajar dentro y los estamos ya trabajando dentro de este proyecto más ambicioso

efectivamente estamos trabajando en dos aspectos que salieron y se aprobaron en el monográfico como

esa radiografía del sector que comentaba como un paso previo y necesario también y de utilidad para la modificación del decreto del actual decreto que regula la comisión consultiva que es esa mesa a la que hacía referencia pero en tanto vamos dando pasos en esta materia

nosotros no por ello dejamos de tener una interlocución fluida con el sector

mecanismos más ordinarios que ya existían como los más novedosos de este año que han sido la creación diferentes comisiones como decía antes y grupos de trabajo para proyectos que estamos lanzando como es la escuela vasca del retail o el propio euskomer que aunque lo gestiona las cámaras pero también participan ya desde este año las federaciones

o de proximidad para decirlo bien y la gran superficie donde debatimos o compartimos temas de actualidad que al sector le interesan

interlocución también es cierto que

se han ido incorporando a los programas y a las acciones otras ya estaban recogidas en el plan director como he comentado antes y bueno

del dos mil veinte como conclusión yo sí también quería destacar que lo que existe es una integración colaborativa del tejido asociativo y gremial en torno a nuestros proyectos tractores

y eso es lo que valoramos también como un gran logro es decir trabajar esa transversalidad y que todos los agentes del sector trabajen juntos y en colaboración también con la administración

asociacionismo y la interlocución permanente ya que abre la puerta a la mejora de los impactos de los programas y las sinergias entre los mismos y por último no quiero olvidarme del importante papel de la mujer en el sector del comercio y en el conjunto de la sociedad por ello el departamento ha impulsado la adopción de criterios sociales

y en los programas los diferentes programas que tenemos el empleo indefinido la incorporación de la mujer en igualdad de condiciones al mercado laboral en concreto hemos incluido el programa

y también acabamos de realizar que lo presentaremos próximamente un estudio sobre la perspectiva de género precisamente en el sector del comercio vasco un estudio muy interesante porque

o ideas prefijadas y nos da una realidad muy interesante del papel social y económico que tiene la mujer en este sector de actividad tan importante por nuestra parte por tanto está el compromiso de seguir trabajando proporcionar recursos formación ayudas programas al sector

y por supuesto reforzar la interlocución con el sector todo ello para ello será de mucha utilidad como decía ese estudio de la representatividad del sector que entendemos que va a ser

muy útil para todos los programas y sobre todo asignación de partidas presupuestarias acabo

con la transversalidad de los nuevos escenarios digitales tenemos consensos muy importantes que se han alcanzado en esta legislatura sobre el comercio nuestras políticas deben ir dirigidas ahora y en el futuro a la consolidación de aquellos proyectos empresariales competitivos

vamos a seguir trabajando y sobre todo en sensibilizar a las personas consumidoras porque siempre que se me preste la ocasión voy a apelar a la responsabilidad también del consumidor y a la nueva forma de consumo que se fije más en el valor de la compra y no tanto en el precio